etorri ezkero kudeatzeko y encontramos en sus intervenciones planes programas e incluso muchas veces lo tengo que decir una apuesta por la transferencia

nunca hemos visto eso cómo se concretaba y eso lo hemos constatado además que incluso cuando

pues tampoco hizo ningún movimiento la consejera para decirnos qué iba hacer pero bueno es verdad que su disposición

planteado y que hemos hecho tengo que constatar que hemos tenido un debate muy rico muy interesante con unas aportaciones muy buenas de todas las personas que han comparecido y a las que les queremos agradecer desde aquí su disponibilidad y el haber estado allí

en este debate nos hemos implicado todos los grupos parlamentarios y que nos permite sacar una serie de conclusiones también

que el departamento de justicia tiene algún estudio tiene algún trabajo o tiene alguna propuesta la verdad estoy esperando impaciente lo que nos tenga que decir para ver

y tenga claro la señora consejera que si vienen de acuerdo con lo que planteamos no vamos a tener ningún problema en decir que lo que se plantea es adecuado y es correcto en este cambio de política penitenciaria que queremos hacer hay una cosa que quiero dejar clara la institución penitenciaria ha padecido desde sus origines

evidenciando fracasos palmarios en la obtención del objetivo al que supuestamente va dirigida que es la reinserción y

de los derechos fundamentales de las personas en situación de prisión la prisión se ha convertido en un espacio despenalizado en el que con una opacidad total y absoluta se pueden hacer de todo tipo y para hacer un diseño adecuado de esta situación tenemos que hacer un análisis aunque sea muy somero de los datos que tenemos sobre

para detectar las principales carencias y ver las principales necesidades es verdad que no vamos a explicar todo nos vamos a centrar un poquito en los datos que tenemos de la comunidad autónoma y de euskal herria

presos en la comunidad autónoma y doscientos ochenta y cinco en navarra en la comunidad autónoma

es importante porque el índice es muy inferior al del estado español de estos hay que hacer una pequeña corrección porque hay algunos presos con arraigo social aquí que están cumpliendo condenas en el estado y muchos del estado

incluso de clasificación penitenciaria están cumpliendo las condenas aquí si hacemos una traslación de las dos cosas nos quedaría más o menos igual la situación

la tasa es muy parecida a la que hay en europa es bastante igualada a uno de los países más progresistas dinamarca es peor que suecia pero es mejor que la de gran bretaña y también hay que hacer un cotejo de la criminalidad y de la población reclusa

el más bajo de su entorno son muchos los factores que pueden tener que ver con esta situación yo creo que muchos de ellos tienen que ver con los altos ratios policiales

y lo tengo que decir porque hay que hacer las cosas de manera objetiva y así lo entiendo con un sistema de protección social de servicios de medidas preventivas y

en muchos ámbitos que hace que esta tasa sea inferior la reincidencia es pequeña es verdad que es todavía de un seis por ciento pero también es verdad y así nos lo dijo el consejero de justicia de la generalitat catalana cuando vino consejero carles mundó que esa reincidencia era mayor cuando se había cumplido íntegramente la pena que cuando se habían planteado medidas de otro tipo en el reparto por cárceles los mil trescientos veintidós presos

hay un treinta por ciento de extranjeros con realidades muy complejas

hay ciento veintiséis mujeres sesenta y nueve en régimen cerrado el nueve coma cincuenta y siete por ciento del total y

centros penitenciarios tenemos basauri y martutene con problemática específica totalmente

en lo que tiene que ver con las infraestructuras hay madres con hijos e hijas de menos de tres años ellos o trasladadas a las cárceles del estado español hay un cinco por ciento de personas muy mayores y hay un veinte por ciento de jóvenes entre dieciocho

creemos nosotros y nosotras que merece atención especial a las personas con grandes condenas que son gente que tiene condenas de larga duración

y también hay una cuestión que queremos poner encima de la mesa porque es importante el sesenta por ciento de todas estas personas son autores de delitos

o cuestiones de esta categoría estos son algunos datos que creemos que hay que poner encima de la mesa porque son los que tenemos que interpretar

una política penitenciaria adecuada madura que prefiera mirar a los ojos a la población reclusa más que meterlos en unas cárceles

como si los tuviéramos en el patio de atrás de nuestras casas tapados ocultos a la vista de la ciudadanía una política que trate con dignidad

antes de abandonarlas una política en clave de derechos de estas personas

printzipioak eta eskubideak el respeto de los derechos humanos tiene que ser el objetivo la visión

de las comparecencias y que también es un debate social entendemos que puede ser una salida pero también vemos que en la sociedad en la que estamos este debate

en cualquier caso tenemos principios inspiradores

los principios y los derechos y cuáles hemos escogido nosotras nos hemos inspirado en las reglas de mandela así denominadas que son en su nombre de verdad las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos de naciones unidas también nos hemos inspirado en las resoluciones del consejo de europa

aboga teniendo en cuenta todas estas cuestiones por la intervención del derecho penal por la más rápida y eficaz resocialización de las personas por el respeto a los derechos humanos conjugando los derechos de las víctimas y la reparación no se debe identificar nunca desde nuestro punto de vista ejecución penal y por eso creemos que hay que proponer medidas importantes y alternativas a la pena de cárcel horregatik eta ikusten dugulako

harremanak todo esto lo hemos convertido en una serie de medidas en una serie de medidas

explicar todas pero tendremos más oportunidades de señalar cuáles son las medidas que hemos

pero sí quiero destacar algunas por la importancia que les damos y por lo que creemos que tienen que ver con ese diseño

egokitzeko el consejero de justicia de la generalitat de cataluña nos decía que si tú quieres hacer un cambio en el modelo penitenciario también tienes que cambiar las formas de hacer las cosas y nos decía que los que vienen de un modelo concreto tienen que hacer un reciclaje bueno pues planteamos un poco

nos parecen importantes también planteamos medidas en relación con las cárceles con cómo están ahora

y planteamos la creación de un centro de cien plazas para mujeres y la creación de otro centro de cien plazas para menores de entre dieciocho y veinticinco años

y creemos que eso se tiene que volver a reflexionar sobre ello planteamos medidas en relación con esa cuestión

en relación con el tratamiento penitenciario

tenemos que buscar el tratamiento penitenciario más adecuado para realizar el camino de la resocialización y pensamos que se tiene que reformular

en módulos no solamente en base a los grados penitenciarios sino con una determinación del perfil el tipo de delito el tiempo de condena el estado de salud y programar servicios y programas concretos para ellas y hay una cuestión

intervención para la progresión del primer grado al segundo para poder estar en régimen ordinario de vida en la prisión de la forma más eficaz posible

estancia de los presos en los lugares de origen así como proximidad de las prisiones a estos lugares de origen con transporte y accesibilidad

porque evidentemente somos conscientes de que las instituciones europeas

resolución de los conflictos en el marco de la justicia restaurativa creemos que estas medidas hay que también potenciarlas y potenciar el servicio de atención a la víctima pero como decía creemos que la solución no es la prisión sino medidas alternativas

creemos que hay que acometer con urgencia la reducción del porcentaje de la población encarcelada en régimen ordinario

abierta al menos al cuarenta por ciento de las personas

preciso un programa estratégico para llevar adelante este reto

y habrá que plantear medidas de sustitución de las penas estableciendo las condiciones necesarias para ello y cómo lo vamos a evaluar y se profundizará en medidas alternativas en relación con la cuestión del trabajo

planteamos crear un organismo autónomo para el trabajo y las prestaciones penitenciarias que ordenará las relaciones laborales de las personas reclusas y que tendrá en cuenta el cálculo de lo que tienen que ser los salarios y todo lo que tiene que ver con la seguridad social eta

entonces creemos que con esto es preciso establecer competencias de subversión y control legislativo sobre el correcto funcionamiento de este sistema de acuerdo con esas asociaciones con un seguimiento de la comisión de justicia del parlamento hau da gutxi gorabehera planteatzen duguna baita ere guzti

dotación presupuestaria dinero para hacer todo esto hemos hecho un cálculo de lo que se puede y se necesita y creemos que es posible acometer

y conseguir que nuestro sistema sea diferente sea mejor sea respetuoso con los derechos de las personas en definitiva hacer un sistema

sea mucho mejor para todas las personas en situación de prisión ellos y ellas se lo merecen pero también nuestra sociedad besterik ez eskerrik asko eskerrik asko goirizelaia

bien voy a comenzar la intervención en nombre de mi grupo de la misma manera que la comencé cuando se pidió la creación de una ponencia sobre este asunto y es si realmente

está este asunto yo no digo que no preocupe yo no digo que no haya que ocuparse del mismo lo que digo y lo que

pero no en pleno para hablar de política penitenciaria porque nosotros consideramos que la responsabilidad de este parlamento es debatir las preocupaciones de los ciudadanos sí pero dando a cada uno

a los temas y existen cuestiones que traen de cabeza a la sociedad vasca pero que no ha merecido un pleno monográfico ni una solicitud por su parte señora goirizelaia por ejemplo el tema de la naval que es verdad

pero desde luego ningún pleno monográfico al respecto el tema de la educación concertada que trae de cabeza

a muchos padres y que desde luego está en el centro de preocupaciones de muchos

de nuestra sociedad vasca y que sin embargo pues como digo tampoco ha sido objeto de un pleno monográfico sin embargo hoy venimos aquí

para usted es un tema partidista y político para eh bildu es un tema

de esta cuestión es una cuestión política es una cuestión en la que no vuelven ustedes a colocar en el centro

yo no sé si en las encuestas de la sociedad vasca la situación de la población penitenciaria que es importante de la que nos debemos ocupar aparece como en el top ten

de las preocupaciones de la sociedad vasca sin embargo para ustedes sí es una preocupación pero fundamentalmente

porque quien promueve esta convocatoria sigue que ha hablado además de víctimas

siguen ejerciendo de representantes de una banda terrorista que fue derrotada por la sociedad vasca pero una banda terrorista de la que no reniegan y hoy estamos aquí convocados para hablar de política penitenciaria fundamentalmente aunque usted no lo ha dicho en su primera intervención pero no hay más que ver la rueda de prensa que dieron

de las primeras medidas concretas a quienes van dirigidas ustedes no consiguieron hacer la ponencia como ha dicho y pidieron las comparecencias o sea lo han hecho por la puerta de atrás aunque se les dijo

idea de cómo hacer y que desde luego iba a escuchar las aportaciones de la sociedad de los grupos políticos pero ustedes querían su protagonismo es verdad que en ese momento lo compartieron con elkarrekin podemos y ahora

con un documento que quiere hacer las veces de un documento de gobierno

pues se refieren a lo que se refieren no sé si ustedes han visto una película española que se llama por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo pues ustedes

pues les aconsejo verla porque el cine español es divertido y esa película en concreto es bastante divertida

porque no lo ha hecho en la primera intervención sí lo ha dejado ahí

mucho más claros dicen que se tienen que traer todos que tiene que haber un decreto de todos los presos

de motivación política y dicen ustedes y les llaman sin ningún tipo de arrobo sin ruborizarse presos de motivación política no señores de bildu se lo he dicho en muchas ocasiones pero se lo quiero reiterar no son presos políticos

los presos de eta están en la cárcel por delitos muy graves por asesinar por extorsionar por secuestrar por colaborar a aniquilar a una parte importantísima de esta sociedad

del resto de la sociedad española por intentar acabar con todos aquellos que no aceptábamos su proyecto totalitario por eso están en la cárcel y no por hacer

sin aceptar que lo que podían hacerlo no lo podían hacer bajo ninguna

reinserción cuando muchos de ellos colocados en la misma tesitura volverían a hacer lo mismo ustedes quieren controlar la situación

penitenciaria de esos presos y lo que hacen es envuelven en embalaje y palabrería

su foco su centro de preocupación es esa porque ese es su objetivo ustedes necesitan escenificar

pero que se siguen ocupando de sus presos de unos presos que como digo desprecian la vía legal para rebajar

la petición de perdón el reconocimiento de culpa y la colaboración con la justicia y ustedes se ocupan de los presos eso sí cuando les ponen delante la exigencia de condenar el terrorismo de rechazar a eta y a su trayectoria vuelven la espalda como hicieron el lunes sebastián señalando que no pueden reconocer que fue injusto porque ese lema según ustedes les excluía y desde luego pues qué decir de un grupo político al que

le parece que fue justo y que no puede participar en una concentración porque no puede compartir el lema de que matar a alguien por pensar diferente fue injusto y usted hoy aquí viene a reclamar una nueva política penitenciaria se lo dije cuando propusieron

la nueva política penitenciaria no es posible hacerla aunque la transferencia venga aquí muchas de esas medidas que ustedes proponen no es posible hacerlas aunque la transferencia

porque eso es competencia exclusiva del estado con arreglo a lo dispuesto en nuestra constitución al ciento cuarenta y nueve punto uno punto seis concretamente

la legislación penal como la legislación penitenciaria corresponden exclusivamente al estado es cierto como le dije en aquel momento que con arreglo a lo dispuesto en el estatuto

régimen y funcionamiento de las instituciones de protección y tutela de menores penitenciarios y reinserción social conforme a la legislación penal y penitenciaria competencia estatal y con arreglo al doce punto uno le corresponde la ejecución como décimos de la legislación penitenciaria del

competencia que hay que decirlo durante mucho tiempo no intereso al gobierno vasco por los problemas que la misma conllevaba desde luego la existencia de una banda terrorista

situación que a día de hoy en cierto punto todavía se mantiene y normalidad y esta misma semana lo hemos visto que todavía no se da pero la competencia el traspaso de la competencia corresponde acordarla entre los dos gobiernos también se lo dije cuando debatimos la creación de la ponencia o no el gobierno vasco y el gobierno de españa

que repetimos consideramos que hoy todavía no se dan

usted ha dicho la respuesta al delito cómo se debe responder al delito

cómo debe de ser la política penitenciaria la progresión de grados los grados que existen todo eso está definido en la legislación penitenciaria y por mucho que traigamos aquí la competencia las instituciones de euskadi y este parlamento no van a poder

y la competencia de la aplicación corresponde al juez de vigilancia penitenciaria aspecto que tampoco es transferible por lo tanto

nos correspondería la gestión planificación administración y organización de la administración penitenciaria porque como décimos

corresponde al estado tenemos la ley orgánica del poder judicial y el real decreto dos mil once que establece las circunstancias de ejecución de penas de trabajo en beneficio de la comunidad la capacidad de dictar reglamentos de la que habla el documento de bildu únicamente podría tratarse de reglamentos internos de organización

porque el tribunal constitucional en su sentencia treinta y uno barra dos mil diez

se puede atribuir a una comunidad autónoma sino que corresponde también al estado

que con relación a euskadi en dos mil once la secretaría general de instituciones penitenciarias firmó un convenio de colaboración con el departamento de justicia e interior del gobierno vasco mediante dicho convenio a modo de encomienda de gestión en este momento los servicios de penas y medidas alternativas residenciados en dicho departamento y también somos competentes en materias sanitarias social laboral y de educación con relación a los penados

también han sido asumidas por la comunidad autónoma de euskadi luego vemos que competencias para el tratamiento penitenciario tenemos y

criticar el sistema penal y penitenciario español calificado en la iniciativa como anticuado y reaccionario porque

con este pleno no hay más que leer los antecedentes y los documentos y lo ha dicho aquí poner en entredicho la calidad del estado de derecho

y de una de las piezas de ese estado de derecho que en este caso es las instituciones penitenciarias hablan ustedes en su documento de la primacía de la reinserción y la

que solamente existiría en el sistema penitenciario

cuando venga la transferencia como si ya eso no se hiciese pues bien el artículo veinticinco de la constitución impone la orientación de las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad a la reeducación y la reinserción social y ha hablado usted también de los derechos de los penados bien pues también ese artículo establece que

lógicamente de los que vengan expresamente limitados por el fallo condenatorio el sentido de la pena o la ley penitenciaria también todos tendrán derecho

usted hablaba de la maldad o de la no bondad

de las penas de prisión pero es que la propia ley orgánica general penitenciaria ya establece ya dice en su propio preámbulo que las prisiones son un mal necesario pero que evidentemente y así se ha dicho también por algunos comparecientes son necesarias que la finalidad fundamental de las penas

deben de ser la prevención especial entendida esta como reeducación y reinserción social de los condenados sin perjuicio de que también deben prestar fines de advertencia intimidación es decir la prevención general demandada

todo el sistema penitenciario español la finalidad resocializadora de la pena pretende con ello el sistema penitenciario español significar que el penado no es un ser eliminado

un miembro activo aunque esté sometido a un régimen diferente motivado por su comportamiento antisocial no hay que olvidarlo anterior

en prisión y encaminada precisamente esa estancia a preparar su vuelta

de las que entró precisamente para que pueda ejercitar socialmente

el sistema penitenciario español ha ido experimentando una evolución precisamente para intentar hacer de las cárceles un espacio de convivencia capaz de fomentar el desarrollo integral de los internos y con el esfuerzo hay que decirlo de los profesionales y de los propios

y reclusas para intentarse convertir en ciudadanos y ciudadanas integradas

que en su momento fueron condenados por haber cometido

posibilita un cuadro amplio de penas de modalidades y de formas de cumplimiento flexibles y abiertas para llevar a cabo esta finalidad usted hablaba de individualización pero es que el sistema penitenciario español una de sus primeras características precisamente es la individualización científica compuesto en tres grados de clasificación y en la libertad condicional se trata de un sistema más evolucionado que los sistemas progresivos

antes por criterios subjetivos y de evolución personas que por criterios y objetivos como los antiguos sistemas progresivos un sistema más avanzado que otros modelos europeos esta definición y cierro comillas en ese momento

de una entidad prison insider creada por el fundador del observatorio internacional

y como decía cuáles son los principios que inspiran ese sistema penitenciario español que ustedes han pretendido poner en solfa y que parece que va a venir aquí a haber un antes y un después pues bien los principios son en primer lugar como le decía la individualización

se les evalúa y se les asigna un régimen de vida no solamente teniendo en cuenta la pena impuesta sino también su personalidad y el historial delictivo que haya tenido

la progresión de grado es una de las características del sistema

y flexible que puede permitir pasar a un grado superior sin tener que pasar por los inferiores y que en cualquier caso cada seis meses los grados son revisados es verdad que el cumplimiento de la condena allí donde el preso tenga arraigo social es un principio

como es el caso de las bandas armadas precisamente para evitar el control de las mismas y precisamente para favorecer su reinserción y esta medida ha sido

por tribunales europeos sino en momentos más recientes en marzo del año dos mil diecisiete por el tribunal constitucional también rige

telefónicas por escrito personales familiares grupales o íntimas y en permisos de salida los internos usted hablaba

perfectamente garantizado es la administración penitenciaria la que tiene que velar por sus vidas por su integridad y por su salud

ni ser objeto de un rigor innecesario en la aplicación de las normas en este punto quiere hacer ver

en las cárceles españolas viene a ser algo como que generalizado

pone de manifiesto aquí lo que el comité europeo para la prevención de la tortura tras visitas los centros penitenciarios españolas entre el veintisiete de septiembre y el diez de octubre de dos mil dieciséis que hizo una serie de recomendaciones sí que el secretario

a finales de diciembre en el congreso de los diputados dijo precisamente que con arreglo a esas recomendaciones iban a ponerse medidas en marcha sí

van a ser tomadas en consideración señaló textualmente la mayoría de los internos españoles que se encuentran en módulos de régimen ordinario y que fueron entrevistados

no alegaron haber sufrido maltrato físico por parte del personal la delegación del comité valoró de forma positiva el considerable esfuerzo realizado por las autoridades españolas

que reducen la duración de las penas de algunos delitos los centros penitenciarios visitados ofrecen buenas condiciones materiales

en todos se ofrecía a los internos en módulo de régimen ordinario una gran variedad de talleres

además de trabajo remunerado se valora positivamente el programa de módulos de respeto y se destaca que los internos que viven en ellos también estiman positivo convivir en un ambiente

con la que tenemos encima con la sanidad penitenciaria el comité dice estoy citando al secretario de estado instituciones penitenciarias el nivel de los servicios sanitarios de las prisiones visitadas aceptable la dotación de personal sanitario también suficiente en general y sus instalaciones convenientemente equipadas el número de funcionarios de prisiones en los centros penitenciarios era adecuado

de ocupación y régimen por último la delegación del comité observó que en general las peticiones y quejas de los internos eran registradas y tramitadas por las autoridades competentes en un tiempo breve esto no lo digo yo esto lo dice un organismo europeo de prevención

reconocido internacionalmente como uno de los mejores no sé si hoy

aquí se sumarán a esta opinión o pensarán que no que el sistema español aunque en este momento esté

regulado o esté bajo responsabilidad socialista sin embargo aquí se haría mucho

con relación a la protección de la salud precisamente además desde instituciones penitenciarias lo que se pretende es que las comunidades autónomas asuman competencias sanitarias que como décimos aquí ya les tenemos asumidas aquí la población

sanitaria corre a cargo de osakidetza y recibe asistencia

asistenciales que el resto de la población aunque es mejorable como todo evidentemente es mejorable hay que poner en valor la calidad de la atención sanitaria que se presta porque se ha unificado la atención primaria y la especializada y las tres prisiones son centros

y están integradas en sus respectivas organizaciones sanitarias integradas especial referencia es verdad que debe hacerse con relación a la cuestión de la salud o los problemas de salud mental que padece gran parte de la población reclusa

muchos de los comparecientes que han acudido a la comisión aunque también es cierto que no hay unanimidad en cómo hacer frente al tratamiento precisamente de los

que tienen padecimientos en salud mental porque para algunos sería necesario estar integrados en las unidades psiquiátricas de los centros hospitalarios vascos y para otro la creación de centros específicos continuando con los derechos de los internos en el sistema

no es algo que vaya a ser propio de ese sistema impulsado por eh bildu que se preserve su dignidad intimidad es un derecho

derecho al ejercicio de los derechos civiles políticos sociales económicos y culturales evidentemente los que no sean incompatibles con el cumplimiento de la pena y se garantiza la libertad religiosa y de culto y mediando un convenio con confesiones religiosas mayoritarias son derechos

presupuestaria mediante este derecho además se garantizará la adquisicion de habilidades que le prepararán para su vida a la salida de prisión derecho

públicas que pudieran corresponderle incluidas la prestación por desempleo derecho a formular peticiones y quejas ante las autoridades penitenciarias

y derecho a recibir información personal y actualizada de su situación procesal y penitenciaria también se ha hablado aquí de la educación y precisamente uno de los objetivos prioritarios del sistema penitenciario español es ese acceso a la educación se pueden cursar las enseñanzas correspondientes a la formación de adultos con carácter

también se pueden cursar las restantes enseñanzas regladas bien se trate de bachillerato formación profesional

incluso se puede acceder mediante un convenio que existe

la universidad nacional de educación a distancia diferentes carreras universitarias que figuran en su programa de estudios

se realiza a través de convenios de colaboración con las consejerías de educación de las distintas comunidades autónomas y son los propios centros los que son responsables

y con acuerdos entre los responsables de ambas administraciones en educación también se

cuando tuvimos ocasión de visitar el centro penitenciario de también la administración penitenciaria debe garantizar el acceso a recursos sociales que son ya sean competencia de la comunidad autónoma de ayuntamientos diputaciones

que deben de ser coordinadas las competencias que corresponden a cada una de las instituciones precisamente para evitar disfunciones algunas de las cuales se dan en este momento y algunas de las cuales nos contaron precisamente

las madres en prisión también es verdad que tienen que ser objeto de un tratamiento específico y la legislación española contempla

y dado que la estancia de los niños en prisión no es lo más adecuado se han creado unidades de madre que es una

y que tiene el objetivo de crear un ambiente más adecuado para que los niños puedan desarrollarse emocional y educativamente durante el tiempo que tengan que permanecer en el centro mejor y que además favorecer la reinserción social de sus madres

con la creación de estas estructuras lo que se ha pretendido es segregar definitivamente las unidades de madre de los centros penitenciarios independizarlas de los mismos dotarlas de autonomía y desde luego darles un ambiente

no son muchas y es verdad que en euskadi no existen y luego podremos debatir precisamente a la tarde sobre la posibilidad

nos han hecho ver la necesidad de un tratamiento diferenciado a las mujeres en la cárcel porque son lugares masculinizados tratamiento que ya lo tienen también en el sistema penitenciario

pues estas cuentan con juristas psicólogos educadores trabajadores sociales sociólogos personal de interior y vigilancia hablaban aquí de la formación de este personal

está previsto existe un plan de formación precisamente con arreglo a poderse

nuevas capacidades y habilidades estos programas de formación son desarrollados por el área de formación de la subdirección general de recursos humanos al tiempo que además

a los distintos equipos de profesionales y categorías con relación a la infraestructura

del tiempo para permitir adecuarlos a nuevos objetivos

internos los centros penitenciarios hoy no están concebidos como macrocárceles sino divididos en módulos lo cual permite crear espacios que facilita la vida diaria en prisión y así

y espacio para otros programas y de esta manera favorecer la rehabilitación la distribución geográfica de los centros se ajusta a la demanda en cada territorio del estado y existen distintos tipos de internamiento

personales de los condenados a prisión y de su situación penal y de esa manera como décimos existen centros penitenciarios ordinarios centros de inserción social unidades de madre hospitales psiquiátricos penitenciarios y unidades dependientes en euskadi es verdad y ya

porque tendremos ocasión allí de plantear en el debate de las propuestas de resolución qué es lo que planteamos cada uno de los grupos con el fin de

con el fin de responder a esas necesidades tanto de cumplimiento en régimen cerrado como en régimen de

cuestión en la que tampoco los comparecientes se han puesto de acuerdo porque para algunos solo debiera de existir una cárcel

nos vino a decir que eso era una falta de responsabilidad y que tendría que haber centros pequeños pero centros

y recursos del sistema penitenciario de españa porque muchos de los principios o medidas

existen ya existen señora goirizelaia existen

que son mejoras es necesario mejoras en todos los sentidos en el tratamiento sanitario como decía especialmente en aquellos internos con enfermedades mentales en la atención educativa

especialmente de las madres en la agrupación de las familias y como digo haremos hincapié en ello cuando tengamos ocasión de debatir las propuestas de resolución de cada uno de ellos

distorsiones se pueden solucionar desde ya que no es necesario que vengan la

por ejemplo y voy a poner un aspecto concreto existen recursos destinados a penados con vih que sin embargo no pueden aceptar un enfermo con cáncer

de enfermos o servicios residenciales que dependen de las diputaciones porque ustedes se han sumado al carro de estos señores que estoy convencida de que el partido nacionalista vasco hablará de las bondades de la transferencia de la gestión de prisiones y de lo bien que se va a hacer en euskadi cuando tengamos el traspaso de la competencia porque eso va a ser

no hay ni actividad delincuencial en euskadi pero realmente es así realmente el traspaso de la competencia a euskadi en este caso de la gestión supone una mejora

hechos son amores y ejemplos tenemos uno y bien claro lanbide cuando vinieran las políticas activas de empleo iba a ser la revolución qué ha sucedido pues que lanbide es un caos y el objetivo para el que debe de cumplir sigue sin cumplirse luego más autogobierno no siempre coincide con mejor autogobierno muchas gracias

socialista viene a este pleno monográfico con los deberes hechos y pasados a limpio y sobre todo venimos con las ideas claras

sin confundir lo que una amplia mayoría podemos compartir con lo que una parte puede aspirar a tener y es importante ambas cosas cuando desde eh bildu nos propone este pleno para abordar el modelo penitenciario que queremos en euskadi

las actuales y las que queremos asumir en el futuro porque son esas y no otras porque podemos compartir y compartimos

gran parte de la filosofía que nos lo traslada el grupo proponente en su discusión sobre este asunto pero no compartimos de ninguna forma que este pleno pretenda ser utilizado

lo que no vamos a hacer ni ahora ni cuando asumamos las transferencias y lo que no vamos a hacer es cambiar el modelo penal eso se lo ha dejado también yo creo que muy claro y ha estado muy bien explicado y extendido en el discurso por parte de la portavoz del partido popular porque para eso y usted lo sabe también perfectamente

son al congreso de los diputados no confundamos planos porque trasladaríamos una idea equivocada de lo que es este parlamento y porque viciaríamos las propuestas que seguro podemos compartir de una forma amplia en esta cámara y mi grupo cree también de paso que esa contaminación entre la esfera penal

que se podría hacer a quienes en este momento están cuestionando la oportunidad de esta transferencia hacia el país vasco así que el grupo socialista quiere que este debate previo a la negociación de la transferencia para el traspaso sea sobre todo

un concepto de utilidad en el debate porque este traspaso estamos convencidos y así se lo décimos de que se va a dar porque estamos seguros de que tras los próximos comicios va a seguir habiendo un gobierno socialista en españa que va a poder cumplir con ese compromiso y seguro que me conceden esta licencia

aunque van a defender otras opciones políticas también tienen ese intimo deseo y por qué pretendemos que sea útil pues porque al fin y al cabo el grupo proponente también trae de rondón como siempre pues su libro en este caso

el que ensalza su independiente modelo de país no ha sido muy insidioso en eso en su primera intervención no pero usted sabe perfectamente qué es lo que ha presentado como modelo para su resolución posteriormente y lo que ha transformado usted en propuestas de resolución así que vamos a ser prácticos desde luego mi grupo lo va a ser

y este debate señora goirizelaia no es nuevo lo único nuevo de hoy es que le dediquemos un día completo

desde la sinceridad esperamos que sea lo más ampliamente compartidas pero el debate lo sabe no es nuevo lo hemos realizado en plenos lo hemos realizado en comisiones en ya varias

ocasiones y yo voy a leer literalmente lo que dije en esta tribuna en esta misma tribuna en junio del dos mil diecisiete hace ahora ya pues casi dos años

pleno monográfico pues la verdad nos escucha poco yo les decía entonces los socialistas sí sabemos cómo se mejora la calidad de vida de la población reclusa cómo se les garantiza todos aquellos derechos de los que no han sido privados por la sentencia que les condena los socialistas

que es lo que está previsto en nuestra constitución los socialistas sí sabemos cómo hay que ofrecer fórmulas que sin sustituir a la justicia penal propicie la justicia restaurativa los socialistas sí sabemos que es posible colaborar con el gobierno de españa que es el que es y seguirá siendo

es más tanto lo sabemos tan clara tenemos la idea que fue la secretaria general de mi partido idoia mendia

contar con un departamento específico para esta y otra materia la de trabajo

y creemos que esas competencias cuando se logre el acuerdo con el gobierno de españa se gestionen de la manera más completa posible y de la manera más eficaz posible y le digo que sabemos hacerlo porque no concebimos otra política penitenciaria que no sea una verdadera política social y de rehabilitación

de otros grupos políticos y en lo que no nos competa vamos a ser agentes activos para buscar complicidades y acuerdos con el gobierno de españa para lograr una política penitenciaria eficaz en ese fin de reeducación y resocialización aquí cerraría las comillas todo esto lo decía lo decíamos los socialistas lo decía yo en esta tribuna cuando gobernaba el partido popular y lo podemos mantener palabra por palabra a día de hoy también desde esta tribuna porque lo tenemos claro porque creemos en nuestro estatuto porque tenemos vocación social

instrumentos que permitan una gestión de la población reclusa en las cárceles vascas que les permita un mejor cumplimiento de esa previsión de reeducación y de resocialización que nos prevé el artículo veinticinco de la constitución poner en manos de quienes son competentes instrumentos suficientes alternativos distintos amplio elenco que nos habían hablado aquí para que podamos cumplir de una mejor manera

he dicho y se lo voy a repetir y quiero que quede claro población reclusa en las cárceles vascas de esto es de lo que estamos hablando vaya por delante también que los socialistas compartimos la filosofía en torno al arraigo a que los presos cumplan condena cerca de donde tengan su residencia administrativa o su entorno familiar siempre que sirva para el objetivo que pretendemos buscar que no es otro ni debe ser otro que la reinserción pero

este destino no lo decidimos ni lo vamos a decidir nosotros porque esa competencia no es la que se transfiere

que quede claro eso no queda dentro de nuestro ámbito competencial

es cierto tan cierto como que nosotros ya se lo he dicho en varias veces no lo compartimos porque sabemos perfectamente que eso se excede del ámbito constitucional de la legalidad vigente y resulta curioso a mí me ha resultado muy curioso

sobre el papel que podrían jugar los juzgados de vigilancia penitenciaria de los tres territorios y permítame el comentario señora goirizelaia porque no me voy a poder sustraer de él porque cuando leí esto pues la verdad es que me salió una pequeñita sonrisa

eh bildu para defender su modelo penitenciario en su nueva propuesta de estatuto toma como referencia al señor ibarra pero no es el señor ibarra el mismo

acusaron de querer condicionar la acción política precisamente porque opinaba en contra de esa propuesta de la ponencia de autogobierno

pero seguro que ustedes lo van a explicar estupendamente yo de todas formas lo tengo claro tampoco se esfuerce mucho los jueces pueden opinar cuando les dan a ustedes la razón

comprobando en esta cámara en diversas ocasiones tampoco me sorprende en exceso ya solamente me sonrió los socialistas vamos a partir o de donde partimos es de la realidad constitucional según la cual el poder judicial es un poder del estado sin ninguna otra interpretación posible

lo que sí nos permite esa realidad constitucional es organizar un sistema propio de tratamiento penitenciario en términos compatibles con los mandatos constitucionales para poder ejecutar con mayor eficacia las medidas aplicables a las personas presas que estén orientadas a su reinserción

en su turno de intervención dónde estarían hoy los socialistas la verdad es que tenemos un amplio margen de ubicación en este pleno porque entre el infierno marcado de todo mal todo mal por eh bildu y el mundo de yupi marcado o intentado ensalzar por parte del partido popular pues tenemos un margen de colocación el resto de grupos

de problemas nosotros no queremos ni demonizar ni ensalzar

que se pudiera poner en marcha en la comunidad autónoma del país vasco una vez tengamos la transferencia ya ven nosotros lo que creemos que hay aquí es un principio de legalidad

y una vocación muy clara de trabajar con todos los operadores con todos incluidos los juzgados de vigilancia penitenciaria para poder abordar el tratamiento penitenciario de otra manera diferente y me parece importante aclararlo y centrar el debate porque cuando logremos acordar esta transferencia

y penitenciaria va a seguir siendo competencia del gobierno de españa por tanto yo creo que en cuanto a la transferencia el debate para nosotros queda centrado

expresando y yo creo que toda la cámara es consciente de ello euskadi lo que hará será integrar los recursos penitenciarios materiales y humanos en los términos que acuerde los dos gobiernos se lo ha expresado también muy bien

lo que prevé el estatuto la comisión mixta de transferencias y el acuerdo entre los dos gobiernos por cierto algo que no han hecho ninguna de ustedes y que yo quiero

que ahora dependen de una administración y que pasarán después a depender de la vasca para cumplir y hacer cumplir lo que los juzgados determinen yo quiero agradecerles

y porque ellos han sido colaboradores de todos los proyectos que hemos venido poniendo en práctica en euskadi con nuestros propios recursos educativos sanitarios y laborales

para emprender la negociación del traspaso los socialistas es verdad no entendemos el desarrollo del autogobierno como una mera acumulación de competencias nosotros también nos plantemos para qué para qué las queremos

lo que pretendemos es una política integral de rehabilitación social de la población penada que cumple sus condenas en euskadi

sea cual sea la razón que conduce a alguien a la cárcel cuando cumpla su condena y vuelva a la calle lo haga reconociendo su error y con la firme voluntad

a delinquir y es verdad que a pesar de que la administración autonómica aún no cuenta con la competencia transferida no debemos olvidarnos que ya interviene dentro de las prisiones

y muchas otras cosas a partir de ahí ya luego ha ido a su libro y hasta aquí ha llegado yo ya le voy a explicar exactamente estas cuestiones de salud educación y muchas otras cosas

euskadi es de facto responsable de la atención de la población reclusa y de su reinserción

es la capacidad permitirnos tener la capacidad de hacer una política de intervención integral en los centros penitenciarios una capacidad de intervenir de forma integral en todos los ámbitos

ustedes lo saben e incluso sin transferencia hemos podido ir avanzando en ese modelo del que ahora estamos hablando nos podríamos volver a entretener otros lo han hecho en por qué hasta la fecha no se ha cumplimentado el traspaso de las competencias de gestión en ejecución penal

grupo no tiene reparos en coincidir en alguna cosa que señala eh bildu sobre condicionantes ajenos al obligado desarrollo estatutario o porque no ha sido tan siquiera objeto de reclamación

pero se le ha olvidado señalar algo que no es excusa que es una realidad y es que el terrorismo de eta hizo que se establecieran prejuicios y cautelas sobre esta competencia a pesar de que no afectaba en ningún caso a la política penitenciaria ni a las decisiones judiciales sobre la población reclusa que corresponden en cualquier caso a los juzgados de vigilancia penitenciaria pero algún día seguramente entre las muchas reflexiones pendientes sobre lo que ha supuesto el terrorismo en este país se deberá también reflexionar sobre el lastre que supuso para el conjunto de la población reclusa en las cárceles vascas que nada tenían que ver con el terrorismo

o cómo una parte de la sociedad vasca les consideró unos presos de segunda categoría pero

no queremos ni queríamos esto ni queríamos que esto fuera así y lo demostramos con hechos para ello yo le voy a recordar a esta cámara que fue durante el gobierno del lehendakari patxi lópez

recordamos este año cuando los socialistas dimos pasos fundamentales para avanzar en la gestión y tratamiento de la población reclusa en euskadi seguramente lo recuerden porque me lo habrán oído decir en algunas

sobre esta materia fue con gobiernos socialistas cuando se actualizaron los convenios para la prestación de servicios sanitarios

es la responsable de la asistencia sanitaria en las prisiones vascas y fue también entonces cuando asumimos la gestión de los itinerarios de inserción con la puesta en marcha de actuaciones para implementar procesos integrales de inclusión socio laboral

como un elemento fundamental para la inclusión la recuperación el fortalecimiento de lazos familiares que mejorasen las condiciones de estas personas penadas para su reincorporación de nuevo

los recursos de deshabitación para personas drogodependientes los centros de formación y capacitación o los de orientación y acompañamiento para el empleo y fue también entonces cuando asumimos la gestión de penas que se cumplen fuera del ámbito penitenciario las penas de trabajos en beneficio de la comunidad las suspensiones

todo esto lo hicimos desde el convencimiento de que podíamos y debíamos cumplir con el mandato de la constitución y de la ley orgánica general penitenciaria ese que dicen ambas que el fin primordial de las penas

e inclusión social de las personas a ellas sometidas este mandato constitucional y legal exige que las personas condenadas no sean aisladas absolutamente de la sociedad sino que se les reconozcan los derechos propios de ciudadanía

todas estas decisiones que se adoptaron en su momento han procurado que esta comunidad tenga de facto una experiencia de gestión de las penas que es imprescindible

en euskadi cuando culminemos el traspaso de la transferencia y por ello también

durante esta legislatura del departamento de justicia para asumir y gestionar esta competencia en cuanto sea transferida

desde el minuto uno a trabajar en esa esperanza de traspaso a la espera de un gobierno que como el actual

ella va a tener la oportunidad de explicar qué ha venido haciendo qué pretende seguir haciendo y qué modelo ha estado trabajando para cuando cuente con todas las herramientas en sus manos que competen

la tarea desarrollada en estos dos años porque la conocemos y porque sabemos la dedicación que ha tenido todo el equipo de la viceconsejería de justicia

ya ve no partimos de cero por mucho que se empeñen en no resaltarlo o en no contarlo los socialistas antes y ahora aspiramos a lo mismo a que la transferencia de prisiones nos permita ya se lo he dicho desarrollar una verdadera política integral

y de rehabilitación porque nosotros sí que creemos que una sociedad no se hace más segura en función de cuántas personas son condenadas o recluidas sino por su capacidad de prevenir el delito de evitar su comisión y de procurar que quien lo cometió no reitere en su conducta

y reinserción de las personas penadas es lo más adecuado y lo único posible en una sociedad democrática avanzada como la nuestra

en la reinserción social en el que se ofrezcan alternativas

de empleo y sociales se garantice una adecuada atención y tratamiento de la población reclusa que favorezca y facilite su reincorporación a la sociedad

a explicar cuáles son las propuestas de solución que desde el grupo socialista junto el grupo nacionalista vamos a presentar para eso vamos tener un turno

después que tengamos la pausa del pleno para ello y por tanto yo solamente definiré las líneas generales del modelo que nosotros queremos defender

de legalidad de reducción del uso de la prisión de resocialización en el ámbito comunitario de integración de las políticas públicas

no nos diferenciamos tanto en esto que le estoy contando cuando usted estaba interviniendo

en las partes en las que teníamos escritas sobre ese modelo sobre la filosofía de ese modelo es donde podemos

un modelo que apueste por un cumplimiento de penas que contribuya a una mayor humanización que busque la atención personalizada y garantice la asistencia socio sanitaria educativa y formativa por encima del carácter punitivo de la sanción debemos convencer a la ciudadanía de que el trato humanitario de los condenados

sino que nos da credibilidad a los valores en los que queremos reeducar a las personas que provienen mayoritariamente no nos olvidemos de ambientes muy difíciles ambientes de marginalidad de exclusión de pobreza de drogodependencia de enfermedad mental porque este es el sentido de las penas en democracia reinsertar a aquellas personas que han cometido delitos los socialistas defendemos un modelo que potencie el cumplimiento de las penas en régimen abierto que desarrolle una amplia red de reinserción y de apoyo

garantías suficientes para que puedan adoptar medidas alternativas al cumplimiento de la pena en régimen cerrado un modelo que desde la integración de las políticas públicas respete y contribuya al desarrollo integral de las personas penadas que potencie la educación en valores el respeto de la pluralidad y de los derechos humanos

la adopción de hábitos laborales y la mejora de la empleabilidad que garantice un acceso a los servicios de salud en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía

que mejore el tratamiento de las personas con enfermedades mentales y adicciones uno de los problemas que nos han puesto de manifiesto que se está produciendo con mayor intensidad en las cárceles

también en las que nos correspondería gestionar que potencie la personalización del tratamiento tratamientos personalizados y el acompañamiento en los procesos de reinserción

de inserción que facilite el transito en la salida de la prisión que facilite también posteriormente la continuidad de los tratamientos en libertad que favorezca y remueva los obstáculos para el acceso

la perspectiva de género que visibilice y atienda la situación de las mujeres presas porque ellas hoy

mujeres que cumplen sus condenas en cárceles que fueron diseñadas para hombres

con déficits y problemas diferenciados que hacen imprescindible que desarrollemos programas y actuaciones específicas que den una respuesta adecuada a sus necesidades

se trata de prestar atención especial a sus necesidades específicas a sus situaciones particulares porque de lo que estamos hablando es de mujeres migrantes de mujeres mayores de mujeres jóvenes de mujeres con funcionalidades diversas mujeres con enfermedad mental y la respuesta se tiene que dar desde la de todos los

o la carencia de apoyos en la red externa deben ser suficientemente abordados y tratados de forma diferenciada la implementación de este modelo

la renovación y adaptación de los equipamientos que se reciban un esfuerzo de integración y formación

la gestión penitenciaria hacia los trabajos de tratamiento con mayor intensidad a lo que ahora se realiza no hemos de olvidarnos de la experiencia que también tenemos

de cómo también allí están orientando los servicios que se prestan a los trabajos que realizan

visitar uno nos vimos los talleres productivos vimos las zonas de ocio de cultura bueno yo cuando

penitenciario salí con una visión yo creo que bastante más abierta y positiva

para que se conozca cuál es la realidad de las mismas con respecto a las personas que están ahí

y cuál es el objetivo de que esas personas estén ahí no queremos almacenes de personas en el país vasco queremos lugares donde podamos tratar y trabajar con las personas para reintegrarlas en la sociedad con garantía de que no volverán

para nosotros el eje central del modelo de gestión yo creo que eso lo comparto con ustedes debe ser la intervención para rehabilitar y reinsertar ese tiene que ser el eje central

que lo haremos junto con el grupo nacionalista y que les vamos a someter a la consideración de esta cámara nosotros tenemos claro el modelo penitenciario

no es el que le gusta a eh bildu porque nosotros estamos pensando en quienes están condenados en euskadi en este momento aunque a eh bildu sé que le gustaría otra cosa y yo lo que espero

y por tener un debate sincero y real que el planteamiento que realizamos los socialistas junto con los nacionalistas en esta cámara concite el respaldo de la mayoría de los grupos

egun on guztioi estoy contento porque partimos de un posible consenso social importante

que está esperando la sociedad vasca y también de los resultados

de trabajo y justicia y las más de catorce comparecencias que hemos organizado esfuerzo especialmente de la presidenta de jone pero

del mundo de los expertos y expertas en distintas materias del mundo de las entidades sociales que nos han permitido a todos y a todas los parlamentarios y parlamentarias que ahí estábamos tomar buena nota y aprender de la realidad de la

y de las bondades y maldades de la política penitenciaria por eso no es de extrañar que algunas cuestiones que han planteado

sean comunes quiero decir los hemos oído juntos dicho esto voy a hacer una breve exposición nunca más de treinta minutos

al marco político a otro modelo de gestión en el cumplimiento de penas a la realidad penal y penitenciaria

el marco jurídico casi todas las leyes se organizan y desarrollan como pactos de convivencia

o sea todas las leyes tiene una dimensión histórica y depende de los juegos de poder político y social en cada momento para que unas leyes u otras tengan trascendencia cambien o no

así la ley orgánica tres barra mil novecientos setenta y nueve del dieciocho de diciembre del estatuto de autonomía

por mayoría en el parlamento vasco en las cortes generales y en referéndum con una participación cercana al sesenta por ciento el veinticinco de octubre de mil novecientos setenta y nueve votaron si

y doce punto uno recogían la transferencia de las competencias en materia de gestión de prisiones y de la organización de régimen y funcionamiento de las instituciones penitenciarias hasta en ocho ocasiones se ha solicitado desde el parlamento vasco al gobierno español la transferencia de dicha competencia

bien con carácter general listas de prioridades de competencias pendientes o puesta en marcha de comisiones mixtas etcétera etcétera bien con carácter específico

julio de mil novecientos ochenta y tres octubre del noventa y cinco donde se redactó el informe de las treinta y siete prioridades a transferir por unanimidad en este parlamento

julio del dos mil dos noviembre del dos mil tres noviembre del dos mil diecisiete abril de dos mil dieciocho y el pasado veintidós de enero de dos mil diecinueve además de los trabajos que las comisiones

se han hecho sobre el tema de forma reiterada dos

es un acuerdo de la mayoría de la ciudadanía vasca hace ya treinta y ocho años y se ha planteado que se cumpla no debería haber llegado este momento

a veces es hasta molesto y por lo tanto nuestra posición nuestra opinión

el estatuto y su cumplimiento es una ley orgánica treinta y ocho años sin cumplirlo y dependiendo de procesos de negociación que se den en distintas coyunturas el pnv con el pp el pnv con el psoe en distintos escenarios políticos en relación

escenarios que posibilitan otro tipo de negocios políticos

de los derechos civiles de los derechos sociales acerca de la necesidad de su cumplimiento

y la gente a la gente le puede pasar por la cabeza que las leyes las leyes orgánicas las leyes importantes insisto

son motivo de componenda y de acuerdos de oportunidad y no de obligado cumplimiento para todos y para todas como parlamentarios y parlamentarias como gentes que estamos aquí para legislar

así se distorsiona la conciencia jurídica del país la transferencia de prisiones es una ley orgánica que se cumpla

reivindicaciones legítimas por otra parte que se tenían que haber cumplido hace tiempo

y posiblemente varios centenares cerca de un millar de presos y presas vascas más

estamos hablando de que la gente que está privada de libertad por haber cometido todo tipo de delitos desde pequeños robos o hurtos a grandes delitos o asesinatos

en claves de derechos humanos este debate no es solamente los presos y presos

el traspaso de la política penitenciaria va a ayudar fundamentalmente a personas presas por delitos comunes

podrían participar de mejores programas de reinserción social o mejores recursos

no el derecho a la salud no el derecho a la educación no el derecho a la reinserción socio laboral no el derecho a rehacer sus vidas

para eso es necesaria la transferencia para avanzar en este fin

se deben gestionar en clave de cumplimiento de los derechos humanos para todos los presos para todas las presas esa y no otra es la clave de la cuestión que estamos discutiendo

los derechos humanos básicos tres pensemos en otro modelo de gestión del cumplimiento de penas hace falta un proceso de planificación y gestión

pero el gobierno no hace las leyes o qué no hombre no le decía yo es el parlamento el que hace las leyes y el gobierno no tiene una posición sobre el tema no tiene un modelo

de un modelo entonces el gobierno hace las leyes no no

veis que hay un poco de confusión sobre el tema nosotros queremos

queremos proponer al gobierno vasco que tome muy buena nota de las proposiciones que aquí vamos a consensuar para establecer el modelo penitenciario elaborado

tienen privado el derecho a la libertad no el derecho a la salud no a la educación

sus vidas necesitamos otro modelo de gestión efectivamente pero para otro modelo de gestión

pedagogía social hace falta explicar a la población de la forma más minuciosa posible las propuestas de modelo de gestión en el cumplimiento de penas que estamos discutiendo puede crear controversias entre la gente establecer una prisión en espacios urbanos

no es un tema sencillo mediáticamente este tema de la gestión de prisiones pero realmente los presos y las presas fueron condenados a la privación de libertad

o humanamente difícil de manejar y mucho menos a vulnerar las cuestiones básicas de la condición humana desde elkarrekin podemos creemos

tenemos una importante responsabilidad en el cuidado de estas personas porque es un buen indicador de la calidad

la transferencia de la competencia en materia humanitaria es una oportunidad de mejorar

por lo tanto más que una transferencia de carácter político para elkarrekin podemos es una transferencia de un fuerte contenido social la ejecución penitenciaria a nuestro juicio y el de los principales colectivos sociales que atienden a las personas presas con los que estamos trabajando

sobre dos bases y ya se ha comentado la reinserción social de las personas presas

es una oportunidad la transferencia de la gestión penitenciaria

valor añadido a nuestra capacidad de gestión eficaz a nuestra capacidad de gestión humanitaria

hablamos de intentar captar los enfoques más avanzados de las sociedades democráticas más avanzadas en europa desde un enfoque ético para que la sociedad vasca se fije en que son posibles gestiones de carácter humanitaria basadas en los derechos civiles

el problema no es el pp les guste o no

casi siempre al desarrollo de los derechos civiles no es el pp el problema el asunto es que tampoco es

es simplemente necesario para organizar adecuadamente

basadas en derechos que tengan que ver con la mejora

además de nuestro autogobierno de recuperar su valor entre la ciudadanía vasca

que ese autogobierno debe necesariamente ser la base para mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía para blindar sus derechos sociales una verdadera

este es el futuro de la actualización de lo que tenemos entre manos difícil de gestionar cuatro realidad penal y penitenciaria son varios los elementos que deberíamos tener en cuenta cuando hablamos acerca de la cultura de los derechos sociales de los presos y de las presas

la dignidad el derecho a la ciudadanía la legalidad la participación social la calidad de los servicios públicos la integración de las prisiones en las políticas sociales del país la perspectiva de la víctima los derechos laborales los contratos de trabajo

y sin embargo hoy en nuestras prisiones nos encontramos

es la única preocupación del sistema o la más importante esta es la situación y no se trata de negar su importancia sino de buscar que la seguridad no sea incompatible con garantizar los derechos de las personas presas con garantizar los itinerarios de reinserción social cerca de setecientos presos y presas cumplen sus sentencias en la cárcel de zaballa cuando fuimos a hacer una visita el otro día seiscientos noventa y ocho exactamente

con una capacidad de mil doscientos internos aproximadamente otros quinientos

llamamos la atención acerca de la variabilidad de estas cifras porque según nos decía la jueza

hasta quinientos cuarenta presos puede haber nuevos en un año

por el importante movimiento de presos y presas a distintas cárceles

se estima que estén cumpliendo penas entre las distintas prisiones del resto del estado entre las que se encuentra

recogiendo las aportaciones de las entidades de iniciativa social que trabajan en la reinserción de las personas en prisión la transferencia de prisiones nos daría la posibilidad de desarrollar en euskadi una política coherente e integral en materia penitenciaria y nos permitiría intervenir

y régimen interno de las prisiones potenciando la labor que se viene desarrollando por parte de las autoridades vascas en dos ámbitos fundamentales en los que sí tenemos las transferencias

los itinerarios de inserción socio laboral en este sentido hemos de recordad la necesidad de que la cartera de servicios sociales

para atender las necesidades de acompañamiento no solo postpenitenciario sino también penitenciario esto es tanto durante el cumplimiento de la condena

el avance en la clasificación penitenciaria y en consecuencia

atender a la sociedad civil que por medio de las entidades especializadas trabaja en este ámbito demandan un cambio de modelo

basta con la prisión cerrada o el cumplimiento de penas de zaballa

centros de inserción social para atender a las personas privadas de libertad que vayan progresando en sus itinerarios de inserción socio laboral para internos e internas de residencia de álava posiblemente con un centro de reinserción social sería suficiente más los pisos de acogida ubicados

hablando de un modelo penitenciario propio consideramos importante pararnos en la labor desarrollada por el servicio vasco de gestión de penas

una labor que en la que nuestro gobierno ya tiene plena competencia no solo nos referimos a sus intervenciones directas sino también y muy especialmente a las sinergias que genera con la red de entidades de iniciativa social que trabajan en el sector

dos líneas de actuación al respecto en primer lugar sabemos que se han superado

y la previsión es que vayan en aumento sino se produce un refuerzo correlativo en sus medios existe un riesgo real de deterioro de la calidad del servicio ofrecido lo que incidía negativamente en el logro de una parte importante de los objetivos estratégicos que ya se anunciaron

en el dos mil catorce y contemplados en el actual

referente al tema de la justicia restaurativa y de reinserción y en segundo lugar las entidades de iniciativa social a las que creemos obviamente hay que hablar con ellas hay que invitarlas a los procesos de gestión y planificación del modelo

efectivo en su proceso de si inserción socio laboral es de valorar positivamente por tanto

que son aproximadamente unas veinte entidades sociales de apoyo a presos y presas donde está la cruz roja

bidezari etcétera etcétera gizakia fundazioak eta besteak esperamos que ello contribuya

así como a consolidar la realidad penitenciaria como parte de la agenda en las políticas sociales cinco el objeto de las penas

no podemos dejar de lado la cuestión de las penas de prisión si la propia constitución afirma en su artículo veinticinco punto dos

y las medidas de seguridad están orientadas hacia la reeducación y la reinserción

son mucho más largas que en tiempos predemocráticos y que en los países de nuestro entorno no siendo el territorio español un país inseguro

se cometen pocos delitos y muy pocos son violentos digan lo que digan los medios de información en el dos mil dieciocho la tasa de criminalidad en el estado fue

por mil habitantes y en la comunidad autónoma del país vasco treinta y ocho coma tres delitos por mil habitantes nuestra tasa de encarcelamiento

la duración de las penas más del doble de la media europea y contamos con una política penitenciaria de unas

cuando lo que correspondería a su tasa de criminalidad sería

un sesenta por ciento de las personas encarceladas en nuestro país no presentan delitos que generan una gran alarma social siendo estos de tipo patrimonial y de mediana gravedad

en los cuales hay una base donde las condiciones socioeconómicas la pobreza inducen al delito cometido muchos de ellos además por personas que presentan

hacia el objetivo de reducir el número de personas encarceladas sin que aumente la criminalidad y esto es apostando por otros mecanismos alternativos a la prisión se han comentado ya como son la mediación el tratamiento terapéutico los trabajos en beneficio de la comunidad

estas medidas permitirían reducir la reincidencia algo de lo que se beneficiarían tanto las víctimas como la sociedad en su conjunto

las personas que sufren enfermedades mentales no deben estar en la cárcel porque no es el lugar idóneo para su total curación evolución y desarrollo manifestado en el veintisiete congreso de la sociedad española de psiquiatría legal celebrado en bilbao recientemente

con un seguimiento frágil por el sistema público de salud trastornos de personas

dependencias psicosis la mayoría de los trastornos mentales denominados graves

atiende a este colectivo la droga entra y circula libremente entre los reclusos de cualquier cárcel del país incluyendo

generando en ocasiones nuevos drogodependientes de los que antes no lo eran parece

primero mejorar la calidad y los recursos disponibles para la atención a estas personas segundo desarrollar el tratamiento en el ámbito comunitario tercero que se tengan en cuenta las necesidades del paciente y de sus familiares de forma singularizada cuarto

penitenciario sanitario y social y quinto que los planes de abordaje terapéutico se enfrenten a la discriminación y al estigma de la enfermedad mental y de la privación de la libertad el filosofo francés

comenta acerca de la prisión y su papel social las prisiones no disminuyen la tasa de criminalidad la detención provoca reincidencia e incluso fabrica delincuentes los

van a tener mucha dificultad para que la sociedad les la presión hacer caer en la miseria a la familia del detenido

ahora bien a pesar de estas críticas la prisión se ha seguido defendiendo como el mejor instrumento el menos malo de pena siempre de cumplimiento de pena siempre que se mantengan ciertos principios ya prácticamente

la transformación del comportamiento del individuo principio de clasificación las personas detenidas deben estar repartidas según criterios de edad disponibilidad procedimientos terapéuticos y o pedagógicos que va a utilizar con ellos y las fases de su evolución

el desarrollo de las penas debe poder modificarse de acuerdo con la individualidad de la persona detenida principio de trabajo como obligación y como derecho el trabajo debe ser uno de los elementos esenciales de la transformación

principio de educación penitenciaria la educación el proceso educativo de la persona detenida es una precaución en interés de la sociedad a la vez que

el régimen de la prisión debe ser controlado por un personal especializado que posea la capacidad ética y moral y técnica para velar por la buena formación de los individuos principio de las instituciones ajenas la prisión debe ir seguida

del antiguo detenido la realidad actual de nuestras prisiones es la suma de los viejos problemas y de los más reincidentes aparición de nuevas drogas con efectos muy patológicos

hacia la marginación a amplias capas sociales los aumentos de desigualdades sociales los desajustes administrativos en el llamado sistema sociosanitario que pueden alterar de hecho la cohesión social o la incomprensión y dificultad en el

en este contexto es necesario reflexionar sobre las alternativas de los procesos terapéuticos a estos pacientes el proceso

que se ensayó hace años fue positivo y ha sido un fallo en las alternativas comunitarias y de estructuras intermedias lo que ha causado importantes disfunciones y desatención

en el endurecimiento del código penal y en la insuficiencia de alternativas a las penas privativas de libertad llena las prisiones

de personas con diversas adicciones y otras patologías mentales

es cerca del diez por ciento ocho por ciento en el estado español

es decir en euskadi doblamos la media europea de mujeres reclusas muchas de ellas cargan con un historial de abusos psicológicos físicos y sexuales

sufren además problemáticas añadidas a su condición de estar en prisión

suelen presentar una mayor desestructuración y proceden de ámbitos de mayor pobreza

más de la mitad de las mujeres actualmente en prisión han consumido drogas los delitos previos de machismo son habituales y el ochenta por ciento aproximadamente tienen hijos e hijas

lo son por delitos contra la salud pública drogas y contra la propiedad pequeños delitos las que son madres en prisión

o trasladadas a prisiones con unidades para madres los espacios son inadecuados sería necesario y conveniente crear unidades aquí en euskadi para que esto no se produzca equipamientos comunitarios y otro tipo de pisos protegidos y dependientes

no son suficientes los centros de inserción social que tenemos no hay habitualmente recursos específicos para madres que están en prisión con carácter general

es necesario y conveniente elaborar o fortalecer los protocolos para funcionarios y funcionarias en relación con el trato no machista

en el acceso a la salud a la educación al trabajo a las condiciones de reducción de penas y al proceso de relación entre madres antes y después de los tres años de edad es fundamental respetar la cadena de afectos y por eso una formación especializada y unidades específicas son esenciales

no podemos terminar nuestra intervención sin referirnos al colectivo de personas privadas de libertad por delitos de terrorismo

pero sin duda su situación genera una evidente preocupación social y política a la que nuestro grupo

tanto el ararteko como múltiples agentes sociales y políticos han venido manifestando su criterio favorable a un cambio en el tratamiento penal y penitenciario de los delitos de terrorismo en los mismos términos de defensa de los derechos humanos de todas las personas privadas de libertad

teniendo en cuenta que el año no ha registrado avances significativos al respecto

cumplan su condena en cárceles próximas a sus lugares de origen
para satisfacer un triple objetivo favorecer su reinserción social tal como exige el ordenamiento jurídico isiltasuna mesedez evitar el desarraigo social de los penados y

y acabar con los efectos negativos costes y riesgos

que el alejamiento comporta para familiares y amigos y amigas que no son justificables

y que son perfectamente evitables en la actual situación por otra parte venimos pidiendo de forma reiterativa que la administración penitenciaria facilite la aplicación de normas legales

y debemos también reiterar la petición de que eliminen las disposiciones especiales relativas

la concesión del régimen de tercer grado y el acceso a libertad condicional

excarcelación de personas que padezcan enfermedades incurables o graves

tres circunstancias que aplicadas en el plazo más breve posible de tiempo nos deben conducir a un nuevo escenario de normalidad

que este país necesita para avanzar en la senda de la convivencia tenemos pues

personas a secas personas con dificultades personas que han cometido delitos y que están pagando por ello pero son personas no lo olvidemos sujetas a derechos

otra oportunidad personas con dignidad con derechos sociales y civiles personas a las que esta sociedad

ereduari buruz izenaz en el documento presentado públicamente por eh bildu el pasado

del que posteriormente se nos dio traslado a los grupos parlamentarios y que hoy ha servido de guía a la intervención de la señora goirizelaia en primer lugar se preguntan por qué y por qué ahora

de la competencia penitenciaria y no es mala la pregunta cuando en un tema tan serio realmente se lleva mucho tiempo reflexionando y trabajando por qué ahora eh bildu plantea este debate este debate sobre una transferencia recogida en el estatuto de mil novecientos setenta y nueve es decir hace cuarenta años ahora nunca es tarde y bienvenidos

pero entendemos que en este caso como decía parece una excusatio

de la organización régimen y funcionamiento de las instituciones de establecimientos penitenciarios y de reinserción social y por su parte el artículo doce punto uno dice que corresponde a la comunidad autónoma del país vasco

eh bildu habla de que el principal obstáculo para la gestión penitenciaria es la sistemática negativa de los gobiernos españoles de turno alegando en la mayor parte de las ocasiones motivos de oportunidad

aunque quizás también echamos en falta algo de autocrítica ya que evidentemente el fenómeno del terrorismo ha condicionado mucho la política penitenciaria en este país y dicen

que también hay que destacar la actitud de los gobiernos vascos previos desechando dicha competencia habiendo renunciado a cursar de manera exigente esta reclamación

que ha sido dilatoria dubitativa y frustrante lo cual además de incierto es totalmente injusto

dubitativa y frustrante parece que echando la culpa a otros quieren quitarse

la posición del pnv del partido nacionalista vasco y de los gobiernos en los que ha formado parte siempre ha sido la misma en esta materia desde el uno de febrero de mil novecientos ochenta y ocho

para manifestar su voluntad de iniciar los contactos que condujeran a esta transferencia

y más recientemente con la actualización del listado de transferencias pendientes hasta las manifestaciones de la propia consejera de trabajo y justicia la señora san josé hace poco más de un mes cuando afirmaba en esta cámara en un pleno de control que su departamento está preparado para asumir

y se reafirmaba en lo manifestado en su primera comparecencia en este parlamento allá por el mes de enero de dos mil diecisiete para explicar las líneas generales de su departamento cuando dijo que una de las cuestiones a las que se iban a dedicar

de nuestras cárceles cuáles son sus necesidades y cuál es el modelo que querían poner en marcha con las nuevas herramientas que iban a tener a su disposición esta ha sido la actitud de los diferentes gobiernos vascos además se contradicen porque a reglón seguido dicen que recientemente el gobierno español ha remitido por fin

y no se pregunta por qué por inspiración divina de motu proprio gracias a las gestiones y negociaciones realizadas

español y finalizan este apartado diciendo que en cualquier caso eh bildu quiere impulsar el debate para estar preparados ante una posible transferencia como si hasta ahora no se hubiese hecho nada no se parte de cero en esta materia ni en gestión ni en el análisis y debate en gestión tenemos experiencias de éxito desarrolladas a partir de las competencias asumidas hasta el momento lo decían

el modelo de justicia juvenil la gestión de las penas alternativas a la prisión

o el de sensibilización y concienciación para delitos contra la seguridad vial la responsabilidad de los itinerarios de reinserción de las personas penadas y los resultados son excelentes en materia de reincidencia tampoco se parte de cero como decía en estudios y debates sobre esta materia si quiere en el segundo turno le detallo

perfectamente de hecho en su documento y en la intervención ha utilizado algunos de ellos

para que el resto de planteamiento que hoy se van a realizar se puedan llevar a cabo y es que el parlamento vasco nuevamente se reafirme en la exigencia al gobierno español del cumplimiento de la ley del estatuto de gernika y proceda a la transferencia recogida en su artículo

todavía ahora con más razón debido a la moción promovida y aprobada recientemente en el senado a instancias del partido popular contra las transferencias pendientes a euskadi contra el cumplimiento de la ley de estatuto

y le corresponde a la comunidad autónoma del país vasco aquí no cabe ninguna interpretación nacionalista al respecto del estatuto más bien en su caso una interpelación nacionalista española parece ser por el contrario llama la atención que la primera de las cien medidas de eh bildu para la gestión de la competencia penitencia en el documento mencionado sea

a los centros penitenciarios ubicados en euskal herria y el segundo bloque de medidas propuestas después de esto por eh bildu en dicho documento antes de analizar la situación de las mujeres en prisión antes que las medidas sobre las infraestructuras funcionarios y tratamientos penitenciarios antes que las víctimas

se refieren a medidas con respecto a la excepcionalidad aplicada a presos de motivación política alegia ez duzuela

solo hay que ver también sus prioridades iniciales en la ponencia de memoria y su programa electoral

sobre esta cuestión y sobre esta cuestión pues ya se ha pronunciado esta cámara y además ha contado con el voto favorable de nuestro grupo parlamentario por mucho que haya cambiado el orden tras ver nuestro borrador y propuestas de resoluciones el pasado lunes pues este parece que es su objetivo y lo varían varían

a la que va destinado compartimos con los proponentes que no queremos la transferencia para seguir haciendo lo que hace madrid que queremos innovar para tener un modelo de gestión penitenciario propio basado como adelantó la señora consejera en la reinserción pero lo que nos diferencia básicamente

mientras tal y como dicen en su documento y hoy ha repetido su portavoz lo plantea en su programa electoral de esta legislatura dos mil dieciséis dos mil veinte para el partido nacionalista vasco es una reivindicación histórica por la que lleva trabajando más de treinta años

legítimo y no lo disimula lo más mínimo el partido nacionalista vasco se fija en la defensa de los derechos de todas las personas privadas de libertad también de los presos y presas de eta

la autodenominada izquierda abertzale a la que su portavoz es innegable que

no ha hecho todavía autocritica del pasado terrorista sufrido por este país frente a eso nosotros pedimos a los presos a todos y a todas que se responsabilicen

injusto causado y por ello resulta curioso también pero puede tener cierta lógica desde ese punto de vista que en el segundo apartado del documento antecedente únicamente hacen referencia a lo ocurrido a partir de las

remitiéndose al programa electoral de eh bildu para las mismas

no los inmediatos sino un poquito más allá habría que preguntarse que decían los anteriores programas electorales eta ezker abertzaleak alor honetan izandako jarrera zein izan da

aurrekari askoz gehiago daude en lo relativo al diagnóstico de la realidad penitenciaria actual dan una serie de datos objetivos algunos no muy actualizados y hacen una serie de valoraciones unas positivas otras más críticas en las que en algunas podemos estar de acuerdo muchas de ellas como decía la señora goirizelaia provienen de las comparecencias celebradas en la comisión de trabajo y justicia a los que

personalmente en aquellas comparecencias agradécimos sus aportaciones y otras se basan en esos trabajos a los que me refería realizados anteriormente bastante más anteriores

por instituciones o colectivos sociales de la materia y para finalizar este apartado hacen un apunte presupuestario que nos genera dudas en cuanto a su fiabilidad y rigor

pero no obstante sí que compartimos que la transferencia exigirá un esfuerzo presupuestario a título de ejemplo únicamente como modo de referencia

y en el dos mil diecisiete trescientos sesenta millónes de euros en gestión penitenciaria por lo tanto

este esfuerzo presupuestario no tengo dudas de ello pero también es cierto que se necesitará lógicamente del apoyo parlamentario

en los presupuestos generales de la comunidad autónoma desconocemos si desde eh bildu

y finalmente respecto a los derechos y principios inspiradores de una política penitenciaria vasca compartimos gran parte de lo que se afirma en el documento ya que son derechos y principios

internacional si bien sí que echamos en falta reitero que sobre esas afirmaciones se haga un ejercicio un mínimo ejercicio autocritica del daño causado injusto

y desde nuestra creación como partido hace ciento veinticuatro años reivindicamos lo mismo todos los derechos humanos para todas las personas y en esta línea presentaremos nuestras propuestas de resolución que lo haremos conjuntamente con el grupo socialista y lo haremos esta tarde

para nuestro grupo parlamentario euzko abertzaleak las líneas generales del futuro ejercicio de las competencias previstas en el estatuto en materia de servicios penitenciarios se deben fundamentar

apueste por un modelo basado en la dignidad y los derechos de las personas pertsonen duintasunean eta eskubideetan oinarritutako eredu baten aldeko apustua

el respeto a la dignidad de las personas víctimas y victimarios en su sentido más amplio debe constituir el eje y límite infranqueable de la ejecución penal y penitenciaria

de sus derechos fundamentales la legislación penitenciaria internacional dice que la pena privativa de libertad debe consistir únicamente en solo

sin añadir sufrimiento alguno por ello es necesario humanizar la estancia de las personas internas en las prisiones

hay que hacer una especial referencia a las mujeres en prisión que aunque es un colectivo minoritario

con los países de nuestro entorno y teniendo en cuenta que la política penitenciaria ha sido diseñada para el preso mayoritario que es el varón

la desigualdad y la discriminación dentro de las prisiones no hay diferencias en cuanto a los deberes pero sí en cuanto a los derechos y por ello es necesario trabajar con perspectiva de género

el modelo que proponemos quiere potenciar la perspectiva de la víctima y la reparación en el sentido más amplio garantizando a la víctima todos los derechos que recogen las normas internacionales y la legislación interna en el marco de una justicia restaurativa los estudios demuestran que estos mecanismos de justicia restaurativa son más exitosos que la prisión a la hora

además de ser un derecho penal más justo más respetuoso con los derechos fundamentales y más efectivo en segundo lugar debe basarse en la garantía de los derechos civiles políticos económicos sociales y culturales de las personas privadas de libertad

entendemos que a excepción de las limitaciones que son necesarias para el encarcelamiento y la consiguiente pérdida por tanto de libertad las personas privadas de libertad deben seguir gozando

las personas encarceladas deben de disfrutar de manera efectiva de todos los derechos que no hayan sido limitados por la condena en este sentido el modelo penitenciario de noruega que es una referencia en esta materia demuestra que tratar a los presos como seres humanos funciona con tasas de criminalidad muy bajas y tasas de reincidencia inferiores al veinte por ciento su argumentación es muy sencilla de una manera un poco burda pero clara dicen

en tercer lugar se debe apostar por la oferta de oportunidades de inserción adecuadamente individualizadas con las infraestructuras equipamientos y personal necesarios a este fin

y lo que propugna la legislación penitenciaria internacional en el sentido de que la ejecución de las penas

la reeducación y reintegración social del delincuente la mejor forma de llevarlo a cabo es

apostar por el uso de las medidas alternativas de carácter terapéutico restaurativo y comunitario con una atención personalizada como camino a que esa reeducación y reinserción social instaurando un sistema penal más humano

de los derechos humanos y libertades fundamentales y también con menos costes humanos sociales y económicos y en esta materia de resocialización hay que destacar y valorar

las entidades del tercer sector preocupados y ocupados en trabajos de apoyo a las personas

para garantizar los objetivos de su reeducación y reinserción y reducir su estancia en prisión y que además

contar con un soporte fiable de recursos sociales para desarrollar las fórmulas que la ley posibilita en materia de tratamiento y cumplimiento alternativo

que trabajan de cerca en el ámbito penitenciario como mejor se conocen

con vista a su reinserción y en cuarto lugar finalmente debe basarse también en la actuación interinstitucional coordinada para la atención a la diversidad de problemáticas que afectan a las personas privadas de libertad la reinserción social

desde una perspectiva de cogestión interdepartamental y también de cogestión

por lo tanto dentro del gobierno vasco no solo le corresponde al departamento de trabajo y justicia que deberá liderar esa coordinación sino que es también competencia de los departamentos de salud educación empleo y políticas sociales y a nivel interinstitucional

como las entidades del tercer sector para la concreción de los fines y medios idóneos para la ejecución de las penas y medidas de seguridad

y formativa a fin de buscar el fin último de su reeducación y reinserción social y a pesar de no contar con la transferencia el gobierno vasco lleva años trabajando para mejorar

con la transferencia entendemos que esto se va a mejorar sustancialmente así el departamento de educación realiza una importante función de alfabetización recualificación

y competencial de la población reclusa a través de la educación de adultos la formación profesional o los estudios universitarios como dato de interés durante el curso

hay matriculados en la educación permanente de adultos en las tres prisiones de euskadi un total de quinientos dieciséis personas casi un cuarenta por ciento de la población reclusa total

comunidad autónoma producida la transferencia en dos mil once se ha conseguido el objetivo fundamental que era integrar la atención sanitaria penitenciaria en la comunitaria

con las mismas coberturas estructuras y herramientas que las prestadas a la población general ya que entendemos que la condena no supone una atención sanitaria diferenciada incluso

personal sanitario en los tres centros penitenciarios de euskadi martutene zaballa y basauri para una población reclusa de algo más de mil trescientos personas

de siete mil quinientos personas no llega a la mitad de personal sanitario es decir esto es lo que

está garantizado por lo tanto el departamento de salud en un proceso pionero ha conseguido

mejorando la calidad asistencial a las personas privadas de libertad y está trabajando en colaboración con las entidades del tercer sector con dos de las problemáticas actuales de las prisiones los enfermos mentales

y también en la mejora del enganche de la prisión con el exterior ese aspecto sociosanitario el departamento de empleo y políticas sociales impulsa intervenciones conjuntas entre el personal técnico de instituciones penitenciarias y de instituciones y entidades sociales para el diseño de itinerarios de inserción que posibiliten una adecuada derivación y propicien el mejor encaje de la persona con los recursos externos respecto a lo que me manifestaba el señor uria una aclaración tanta confusión

las propuestas que hoy se van a plantear y someter a votación no son para que el parlamento haga una ley penitenciaria son para que en atribución de las funciones de control e impulso del parlamento al gobierno se le marquen unas directrices al gobierno que es el competente para ello para diseñar y elaborar el modelo de gestión penitenciaria

se deberán sumar a otras respecto a la señora llanos lo manifestado por la señora llanos nosotros respetamos las iniciativas

cada cual cada grupo decide los temas a tratar el modo y el momento y podrá ser objeto de críticas o no

parecía que no tenía mucho interés en esta materia el grupo popular de hecho se reflejaba en el propio interés de su grupo parlamentario durante su intervención y durante todo este debate y manifestarle brevemente que no coincidimos con su modelo penal y penitenciario y no es ese el modelo penal y penitenciario que queremos para euskadi inicialmente no coincidimos en su actitud sobre la transferencia de la competencia decía cuando se den las condiciones para ello y quién interpreta cuándo se dan las condiciones para ello el partido popular el gobierno español

es bastante escaso nosotros exigimos el cumplimiento de la ley fuera de toda coyuntura política no aceptamos una visión parcial de esa obligación de cumplir la ley

desde el grupo popular que están cambiando el fin de la pena de prisión pasando del objetivo de la reinserción

como partido humanista que somos no es ese y hacía alusiones al partido nacionalista vasco antes de que me pronunciase la mejor defensa es un buen ataque decía que el pnv hablará de lo bien que se va a hacer no tenga ninguna duda

mire lo que se ha hecho hasta ahora en esta materia en materia penitenciaria sin tener la competencia por lo tanto no tenga dudas sobre ello voy finalizando como decía el ararteko sociedad democrática se caracteriza por pretender que el sufrimiento causado a través de la pena sea el menor posible la más reciente normativa internacional en la materia propugna

de su coste humano social y económico y en consecuencia de la necesidad de poner en marcha modalidades alternativas de castigo que favorezcan la responsabilización personal y la reinserción social todo ello sin olvidar los intereses y los derechos de las víctimas de los delitos y en esta línea hay que trabajar y se está trabajando y por supuesto

el sistema de ejecución penal que definitivamente se implante será la consecuencia de un complejo proceso no lo decidiremos hoy en este pleno es un tema serio y complejo para tener un antes un durante y probablemente todavía

las decisiones que se vayan tomando a las necesidades reales y en este proceso intervendrán todas las instituciones las instituciones gobierno diputación ayuntamientos otros agentes institucionales administración de justicia y sociales sindicatos y entidades del tercer sector

se marcarán cuáles son las líneas que se quieren para un modelo penitenciario de euskadi las reglas penitenciarias europeas y las recomendaciones del consejo de europa dicen que la prisión debería ser el último recurso para responder exclusivamente a los delitos más graves las alternativas a la prisión deberían ser la norma y la prisión la excepción por tanto

restaurativa que no es precisamente la línea que a nivel estatal se está siguiendo con

en los últimos años modelo por tanto dirigido a reducir el número de personas encarceladas donde se garantice el respeto de sus derechos fundamentales salvo los limitados expresamente por la sentencia y a que las prisiones cumplan con los fines de reeducación y reinserción social no sé las veces que he repetido

debemos trabajar para que la justicia penal sea una justicia más preventiva más restaurativa y menos represiva porque será más eficaz y menos costosa y termino con una frase se ha mencionado aquí las reglas mínimas de las naciones unidas para el tratamiento de reclusos las denominadas

una frase que inicia con una foto de mandela el texto dice mandela o decía mandela suele decirse que nadie conoce realmente cómo es una nación

y nosotros al igual que en la gestión de otros servicios públicos de euskadi esperamos la transferencia para ejecutar un modelo penitenciario propio que nos permita presumir y dar ejemplo

egun on guztioi el pasado quince de noviembre de dos mil dieciocho los y las parlamentarias de euskal herria bildu presentaron ante la mesa de esta cámara una iniciativa para que se celebrase este pleno monográfico sobre el modelo penitenciario que debe ponerse en práctica una vez que se materialice la transferencia

no tengo duda de que a la vista del debate que están manteniendo ustedes resultará enriquecedor para definir el modelo penitenciario que se desarrollará en euskadi efectivamente el artículo diez punto catorce del estatuto de

prevé la competencia de la comunidad autónoma del país vasco para la organización régimen y funcionamiento de las instituciones y establecimientos de protección y tutela

y de reinserción social así como para la ejecución de la legislación penitenciaria artículo doce apartado uno si bien lo referido a la protección

las materias concernientes a las instituciones y establecimientos penitenciarios está sin materializarse

muchas las circunstancias que no voy a entrar a valorar y mencionar ahora que han impedido que se cumpliera lo contemplado en el estatuto el acuerdo de gobernabilidad suscrito en noviembre de dos mil dieciséis

que se recoge en el acuerdo de gobierno de euskadi dos mil veinte como uno de sus ejes fundamentales el compromiso de desarrollar e impulsar el autogobierno de nuestra comunidad entre estas prioridades se encuentra la consecución de la transferencia sobre centros penitenciarios que hoy nos ocupa esta manifiesta voluntad política del actual gobierno vasco correspondida por los gobiernos del partido popular hubo que esperar a que hubiera el cambio de gobierno en españa para que se reuniera la comisión mixta de transferencias

se desbloqueara la situación y que por fin el gobierno vasco y el gobierno español establecieran un calendario para materializar treinta y tres transferencias

el gobierno vasco celebramos que haya sido posible el diálogo y el compromiso político entre los dos gobiernos para mejorar el autogobierno desde el respeto a las leyes y a la seguridad jurídica señorías lo que se prevé con este acuerdo es ni más ni menos que cumplir con lo dispuesto en el estatuto y la constitución

no es ninguna concesión ni prebenda y que está plenamente inmerso en nuestro marco legislativo se trata de

es decir las funciones de dirección organización e inspección sobre instituciones penitenciarias así como la actividad penitenciaria de las radicadas en el territorio de la comunidad autónoma del país vasco en el terreno personal y material

y en los bienes inmuebles correspondientes quede claro desde el primer momento

que seguirá como competencia exclusiva del estado y en esta línea seguiremos como gobierno vasco reclamando como prioritaria esta transferencia al gobierno que salga

nuestro marco de actuación está configurado por la ley

modificada por dos leyes en el año dos mil tres la cinco y la seis así como el real decreto ciento noventa barra mil novecientos noventa y seis que regula el reglamento penitenciario

desde el principio del mandato la necesidad de definir el modelo penitenciario a aplicar en euskadi en el momento de la transferencia nuestro modelo apuesta y se compromete con los principios constitucionales y la doctrina europea en la materia y va dirigido al conjunto

sin diferenciar a esas personas por el carácter del delito cometido lo que pretendemos es que todas ellas asuman su responsabilidad y el daño causado partimos del hecho de que las penas las imponen las y los jueces y serán ellos quienes tomen las decisiones sobre el régimen de cumplimiento en cada caso

los medios y herramientas necesarias para que se tomen decisiones con la garantía suficiente y que estas sean las más indicadas para cumplir

social ya les he comentado que tenemos transferida la competencia en materia de justicia juvenil pero también existen otros antecedentes de transferencias como las adoptadas sobre el personal integrado en el cuerpo de maestros que presta servicio en los centros penitenciarios de la comunidad autónoma o sobre la sanidad

también es necesario resaltar los convenios firmados entre los gobiernos vasco y español en dos mil once que nos permiten gestionar todas las penas y medidas en medio abierto

una de ellas ha sido conocer la opinión de la sociedad vasca sobre la transferencia de prisiones para ello solicitamos al equipo de investigación del departamento de ciencia política y de la administración de la universidad pública vasca euskobarometro que la última oleada de dos mil dieciocho incluyera preguntas al respecto los resultados han sido elocuentes y desde nuestro punto de vista

dos de cada tres entrevistados un sesenta y ocho por ciento consideran positiva

negativa esta opinión mayoritaria se refuerza porque se manifiesta en los tres territorios históricos

en todos los grupos de edad en todos los niveles económicos o de estudios entre vasco hablantes y castellano hablantes y en todos los electorados

y ciudadanos el argumento de la mayoría

la confianza en la mayor eficacia de la gestión autonómica como ya les he comentado en alguna ocasión desde el inicio de la legislatura ha sido una pretensión de esta consejera y del área de justicia del departamento contar con un diagnóstico de la situación

de los principios y líneas estratégicas sobre las que debiera basarse un modelo penitenciario en euskadi por ello solicité su colaboración a un grupo de expertos

así como a la secretaría general de derechos humanos convivencia y cooperación un grupo en el que también han tomado parte el instituto vasco de criminología el ararteko así como profesionales del ámbito académico penitenciario y del tercer sector

quiero agradecerles a todos y a todas ellas su dedicación y aportaciones este grupo de trabajo ha realizado aportaciones para la creación

en el departamento estamos analizando esas propuestas

que se basan en valoraciones propias y en el contraste con otras instancias como pueden ser miembros del poder judicial y de la fiscalía asimismo el departamento mantiene

para conocer y analizar directamente su proceso de transferencia las dificultades y la valoración que los responsables catalanes hacen de la gestión de esta competencia no es preciso resaltar la importancia que tiene este pleno monográfico que como está previsto aprobará propuestas de resolución

por tanto en este momento no puedo aportarles un documento cerrado pero en mi intervención les voy a dar cuenta de lo que son las líneas generales de lo que será el resultado que obviamente les será remitido una vez ultimado esta es también una buena ocasión para que la ciudadanía vaya percibiendo el modelo por el que apostamos

para definir el modelo partimos de un análisis de la situación actual que tiene tres apartados un diagnóstico de la situación del sistema de penas y medidas en medio abierto de la red que se encarga de la reinserción de personas penadas y del sistema penitenciario de régimen de internamiento

como he comentado antes el convenio firmado en dos mil once entre la consejera de justicia del gobierno vasco y la secretaria de instituciones penitenciarias del ministerio del interior

sea la única a excepción de cataluña que gestiona todas las penas y medidas en medio abierto para ello se ha creado el sistema vasco de gestión de penas

decididamente por la reinserción con equipos multidisciplinares que aseguran el cumplimiento de penas en medio abierto en colaboración con los juzgados de ejecutorias tengo que resaltar que somos pioneros no solo a nivel estatal sino también en europa con programas innovadores como son el programa gakoa

y el programa de sensibilización y concienciación para delitos contra la seguridad vial en el futuro tenemos previsto estudiar la puesta en marcha de otros programas dirigidos a los delitos de odio

y otros otra experiencia positiva que se ha puesto en práctica en nuestra comunidad es que las medidas de seguridad para personas con patologías psiquiátricas se cumplen gracias a la colaboración del servicio vasco de gestión de penas

decía que se cumplen en centros psiquiátricos civiles y en aita menni evitando

de casi el cien por ciento la realidad ha convertido

en una herramienta fundamental con una dedicación profesional impecable pero con cierto nivel de saturación en dos mil dieciocho han sido atendidas por el servicio

quinientos sesenta y nueve mujeres el once coma seis por ciento

el ochenta y ocho coma cincuenta y cuatro por ciento conscientes de esta situación

que adjudicará el nuevo contrato y que posibilitará pasar de veinticinco

con un incremento presupuestaria para dos mil diecinueve de casi uno millón de euros la atención

es otra de las prioridades en euskadi existe una red de entidades del tercer sector agrupadas en la red espetxe sarea euskadi nafarroa muy profesionalizada y competentem que trabajan

de personas penadas la dirección de justicia del departamento de trabajo y justicia convoca anualmente subvenciones a las que acceden las entidades del tercer sector para realizar diversas actividades con las personas

como son salidas programadas y campos de trabajo recursos residenciales y de alojamiento

centros de formación y capacitación centros de orientación y acompañamiento para el empleo a estas actividades tienen acceso las trescientos doce personas

el último elemento de análisis de la situación actual es el régimen penitenciario de internamiento a diciembre de dos mil dieciocho la población reclusa en los tres centros penitenciarios de la comunidad autónoma

quienes están penadas en régimen de internamiento y quienes están en prisión preventiva son mil trescientos catorce personas mil ciento noventa y uno hombres y ciento veintitrés mujeres

resultado una tasa penitenciaria de aproximadamente sesenta personas

es de aproximadamente seiscientos personas entre funcionarios y funcionarias y personal laboral quiero agradecer a todos y todas ellas su compromiso por conseguir la reinserción social de las personas que han delinquido

en situación de desprecio y acoso y arriesgando su vida un recuerdo y reconocimiento especial para los funcionarios que fueron víctimas de secuestro

el centro penitenciario de araba es la cárcel de cumplimiento para personas penadas

de prisión preventiva hay que resaltar que ninguna de estas tres prisiones está concebida para presos clasificados en primer grado de cumplimiento del régimen penitenciario

que sin duda tendrá unas condiciones más adecuadas que las del actual centro de martutene que lógicamente seria cerrado también está previsto que junto al centro penitenciario de zubieta se ubique un centro de inserción social

se contará en la comunidad autónoma señorías la reflexión que estamos haciendo en el departamento parte entre otras cosas dela experiencia desarrollada vía acuerdo entre la administración general del estado y de la comunidad autónoma vasca y de un consenso básico sobre la orientación que se quiere dar a la gestión penitenciaria estos antecedentes junto el análisis de experiencias internacionales de éxitos en la reducción de la criminalidad

los principios sobre los que actuar a la búsqueda de los objetivos señalados también y salvando las distancias nuestro sistema de justicia juvenil es una enriquecedora experiencia que nos aportará a la hora de construir el modelo que

son seis los principios en los que basaremos nuestro modelo de los cuales les puedo adelantar algunos aspectos a modo de resumen el primero es

que incluye no solo a las personas penadas sino también a las víctimas y a las personas allegadas de ambas de él se derivan el principio de humanidad de las penas y el principio de intervención mínima el de humanidad debe garantizar unas condiciones suficientes de habitabilidad

y el mantenimiento de los vínculos sociales de las personas reclusas el de intervención mínima implica que debe evitarse en lo posible el carácter sancionador en las respuestas a conductas dañosas el segundo principio en el que basaremos nuestro modelo es el de reducción de prisión el sistema debe ofrecer a los jueces las herramientas que faciliten el cumplimiento de este principio no obstante la aplicación efectiva del mismo

resocialización en el ámbito comunitario el modelo que aquí se propone supone una gran presencia de los servicios públicos ordinarios en el conjunto de las relaciones penitenciarias lo que intensifica de modo notable el criterio de normalización y orientación a la comunidad la comunidad debe participar

como en los procesos de resocialización en el exterior además este principio conlleva a insistir en la necesidad de que la prisión se habrá al exterior y permita que la vida exterior incida más en la vida de dentro

y garantizando los medios para que las personas penadas se rehabiliten la incorporación de la perspectiva de género es otro principio que asumiremos en el modelo la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres tienen muchos ámbitos en los que trabajar

la ley cuatro barra dos mil cinco para la igualdad de mujeres y hombres aprobada por el parlamento vasco el dieciocho de febrero y la ley orgánica tres barra dos mil siete para la igualdad de mujeres y hombres son referentes normativos a toda organización administrativa a aplicar el enfoque de género en sus relaciones internas y con la ciudadanía la misma situación de la mujer en prisión y el elevado carácter patriarcal de la misma dificulta en la aplicación de estos principios y normas

modelo deberá poner especial atención a las actuaciones dirigidas a las mujeres penadas así como procurar la adecuada formación en materia de género del personal que las atiende

se trata de equilibrar los conceptos de reparación responsabilización y participación de las personas afectadas

a todo el modelo de ejecución penal la participación de víctima

es una de las claves del modelo restaurativo que propugnamos es un modelo que estamos aplicando en el marco de nuestras competencias y que ampliaremos al nuevo contexto una vez ejecutada la transferencia el sexto y último principio es el de la integración de políticas públicas es un principio imprescindible para el cumplimiento

prestados por las diferentes instituciones departamentos del gobierno vasco implicados diputaciones ayuntamientos administración de justicia colegios de la abogacía etcétera y otros agentes sociales para la ejecución de las penas y la consecución de la reinserción social pero paso ahora a describirles lo que consideramos deben ser los objetivos

se debe proponer nuestro modelo penitenciario partimos de la base de que el recurso al encarcelamiento en prisiones debe ser la opción extrema y que debe ser utilizada solo en los casos en los que no exista otra alternativa es un error pensar que la severidad de las penas y el ingreso en prisión reducen la criminalidad

y la reincidencia delictiva por el contrario pensamos que crear servicios preventivos y de reinserción son inversiones que ayudan a crear una sociedad más segura e integrada nuestra propia legislación y las recomendaciones europeas nos inducen a transitar ese camino tenemos referentes internacionales como el caso de finlandia que mediante políticas consensuadas y mantenidas a lo largo del tiempo

para ello se han utilizado medidas alternativas a la prisión y se ha contado con los servicios públicos adecuados el primer objetivo estratégico que nos planteamos es conseguir que la tasa de personas encarceladas se sitúe por debajo de cuarenta

presos habitantes depende del código penal y de las sentencias que dicten las y los jueces quienes vamos a gestionar los centros penitenciarios y sobre todo

debemos procurar unos medios y un sistema integral de reinserción

en cualquier caso una tasa penitenciaria como la propuesta habrá de lograrse de manera progresiva los datos a diciembre de dos mil dieciocho nos dicen que la comunidad autónoma casi en veintiocho por ciento de la población penada están en el tratamiento de tercer grado mientras que en dos mil tres del once por ciento esta evolución ha sido posible gracias a la potente red de reinserción vasca algo que vamos a tratar de fortalecer el segundo objetivo estratégico que nos marcamos es que al menos el cuarenta por ciento de las personas encarceladas

regímenes abiertos es claramente coherente con la legislación española y con las recomendaciones europeas

orientación resocializadora y establecen el principio de individualización de la ejecución de las penas de prisión de forma que cada persona habrá de cumplir la pena

una potenciación de los distintos regímenes de cumplimiento abierto llevará aparejada un aumento del número de personas que terminan su condena

lo cual según los distintos análisis realizados contribuirá a la reducción de la tasa penitenciaria y de la reincidencia diferentes estudios han corroborado que las personas que acaban su condena en libertad condicional

del quince coma siete por ciento mientras que las que no acceden a este régimen reinciden un cincuenta y uno por ciento el último objetivo estratégico es conseguir que la reincidencia de las personas penadas sea menor del treinta por ciento

para lograr esta situación hay que trabajar en dos líneas por una parte fortaleciendo la red de reinserción vasca y en euskadi contamos con un tercer sector con dilatada

y comprometido con la reinserción social y por otra construyendo un sistema de régimen penitenciario de internamiento que trabaje con las personas internas de manera intensiva desde el momento de su estancia en el centro penitenciario ayudándoles a lograr situarse en condiciones de acabar su condena

para la consecución de estos objetivos vamos a trabajar de forma integral en tres ejes a la vez potenciar las penas y medidas en medio abierto

y orientar el internamiento penitenciario a la reinserción estas tres líneas se complementan en la medida que las personas que serán objeto de la gestión penitenciaria puedan estar en unos u otros regímenes de privación

para una política eficaz se señalan como herramientas a desarrollar dentro de nuestro ámbito competencial las siguientes primera

individualizado con especial atención a las situaciones específicas de salud mental adicciones y extranjería pudiéndose incluir otras circunstancias que requieran un abordaje especializado sin olvidar la perspectiva transversal de género también destacar dos actuaciones que tienen que ver con el tratamiento individualizado

el abordaje de las situaciones de salud mental los datos con los que contamos nos dicen que el cincuenta por ciento de la población reclusa tiene problemas psicológicos y el diez por ciento enfermedades psiquiátricas vamos a proponer programas de tratamiento psicológico y psiquiátrico específicos dentro de prisión de manera que podamos facilitar

a la situación de tercer grado y a las actividades en medio abierto la otra situación que nos preocupa especialmente es el de las madres con hijos menores de tres años que se encuentran en prisión

para crear unidades dependientes en las que puedan convivir las madres con sus hijos e hijas también potenciaremos estas unidades dependientes para jóvenes y drogodependientes la segunda herramienta será la planificación de los recursos materiales y humanos

la tercera formación del personal para que su labor se reoriente hacia la resocialización del penado con especial atención a la formación con perspectiva de género

resocializadora requiere de la prestación de servicios públicos como ya se está realizando

así como de todos los niveles institucionales desde ayuntamientos a diputaciones gobierno vasco y poder judicial y fiscalía la quinta sería la integración del tercer sector dentro de la red de reinserción la sexta la

potenciación del servicio de justicia restaurativa junto al de atención a víctimas y especialmente el servicio vasco de gestión de penas que estamos

para que evalúen las posibilidades de que una persona condenada pueda cumplir su pena en medio abierto antes de entrar en prisión y ofrecer dicha evaluación al tribunal para que pueda decidir formas de ejecución de condena más efectivas para la reinserción

lo permita la legislación vigente de este modo queremos impulsar de forma más generalizada la aplicación de los trabajos en beneficio de la comunidad y las sustituciones de condena por tratamientos específicos como pueden ser los de salud mental o

como les he dicho al principio estos son nuestros propósitos qué queremos hacer con la transferencia tenemos claro para qué la queremos fundamentalmente para

es decir para reforzar el carácter resocializador de la prisión

a quienes han delinquido a sus víctimas a las personas del ámbito público del tercer sector que son clave en esta labor y a la sociedad en general para que puedan valorar que una política

mejor más integrada y más segura espero que concluyan con éxito

que nos permitan enriquecer el modelo por lo que he escuchado hasta ahora

puntos por eso les pido que nos centremos en lo que nos une

de que un modelo como el que defendemos requiere de amplios consensos políticos

trascender en el tiempo y a las diferentes condiciones de gobernabilidad que puedan darse por nuestra parte vamos a seguir profundizando y trabajando

que estará abierto a nuevas aportaciones eskerrik asko eskerrik asko san josé

desde que usted dijo que iba a trabajar para traernos una propuesta y nos ha traído esto que nos acaba de contar señora consejera la propuesta que nos ha traído está tan verde tan verde como los asientos del parlamento exactamente igual de verde

erkoreka en esa negociación que haya tenido que hacer

porque claro no hay propuesta entonces creo que eso es un problema mire nos ha dicho algo

importante e interesante destacar el grado de consenso que hay para que esta transferencia y la importancia que la sociedad es muy importante un sesenta y ocho por ciento la considera positiva

en ese once pues igual están algunas personas que tienen un pensamiento diferente lo que hemos oído hoy aquí a la mañana de algunos de los parlamentarios que han hablado pero mire usted ha dicho no sé cuántas veces la palabra diagnóstico no sé cuántas veces analizando y contrastando no sé cuántas veces contactos

en concreto en relación con lo que van a hacer y cómo lo van a hacer

cuando nos ha hablado de principios nos ha hablado de generalidades nos ha hecho manifestaciones en genérico nos ha dicho cosas

donde dicen todo lo que usted nos ha contado individualizada reinserción es que era prácticamente coger aquello y trasladarlo aquí y nos ha hablado de objetivos estratégicos

nos ha hablado de que debe de haber un informe por cierto dónde está el informe nosotros le preguntamos sobre el informe el ocho de febrero y todavía no tenemos informe mire el sistema de este parlamento hace que

todas y todos aquí es el de euskal herria bildu euskal herria bildu ha traído aquí un texto que por cierto se lo dimos a usted copiar es malo también porque usted ha cogido nuestro texto y ha hecho ahí una especie de entresaca de las cosas pero claro lo que pasa es que cuando uno copia normalmente

y a mí me da la impresión de que hoy aquí el gobierno es euskal herria bildu

más de cien ciento veinte casi tenemos y sobre eso discutimos todos y el gobierno que tendría que haber sido el primero tendría que haber traído la propuesta nos la tendría que haber dado no nos trae absolutamente nada

y tengo que manifestar mi absoluta desilusión con lo que he oído

en la realidad todo es algo que se evapora desaparece sin concreción que no podemos agarrar y que no podemos contrastar ni hacer nada

de concreción de cómo hacer las cosas y de cómo llevarlas a la práctica

mire hecha la ley hecha la trampa y ustedes de trampas mire que saben un rato y saben un rato de trampas

y le voy a explicar mire cuando ustedes hacen normativa interna que nadie conoce para los presos enfermos cuando ustedes plantean instrucciones que solamente se dan a los funcionarios modifican todo lo que dice esa ley y ese reglamento penitenciario tan maravilloso que tiene españa

por la puerta de atrás vulnerando los derechos de las personas en situación de prisión y eso es la práctica del día a día entonces no me hable tanto de leyes y de la buena que son

durante el mandato que han tenido pero además mire me dice usted es que se puede hacer de todo con lo que tenemos en vigor pero aquí no se va a poder hacer nada

he mirado las estadísticas más de ciento cincuenta presos fallecidos en las cárceles del estado español más de un diez por ciento de presos en aislamiento

no hay protocolo firmado con la universidad del país vasco para estudios y las progresiones de grado que usted me dice que aquí no se van a poder hacer se hacen allí en función de una cuestión que no tiene mucho que ver con criterios ni de derecho ni con principios generales eso es lo que pasa

y me dice le han querido dar transcendencia pues claro que sí le hemos querido dar muchísima trascendencia por eso lo hemos traído a pleno pero no es el único que hemos traído aquí aquí hemos traído un pleno

los únicos de esta cámara las únicas de esta cámara euskal herria bildu creo igual me equivoco que hemos traído plenos monográficos

pero evidentemente lo traemos porque para nosotras tiene mucha trascendencia y tiene mucha importancia y según la encuesta del departamento de justicia también para la sociedad

qué mal lo hacen qué mal lo hacen porque les critica absolutamente todo el mundo es que les critican todas las organizaciones sociales les critican los jueces en sus resoluciones judiciales les critica todo el mundo un poquito más de humildad

las leyes españolas no son la panacea y aquí lo que tratamos es de con lo que vayamos a tener hacerlo mejor para hacerlo diferente porque es nuestra obligación

de las personas en prisión señora castelo mire

pero somos conscientes de que no podemos sabemos que no podemos lo sé lo sé si ya lo he dicho además en mi anterior intervención que lo que me gustaría era que pasase eso

lo que quiero cambiar es el modelo de gestión y de tratamiento que usted lo ha dicho y para eso es para lo que propongo las medidas coincido con usted en muchas de las cosas que ha planteado pero claro no coincido en una mire mi propuesta es para todos

todas las personas en situación de prisión que tengan arraigo

autónoma vasca todas las que están fuera y las que están aquí no solo para las que están aquí porque mire

de deusto con una condena de cuatro años por qué tiene que estar en topas y no puede estar en basauri para que a su madre que es una señora viuda no no pero eso es lo que estoy pidiendo

a través de los decretos que estamos planteando que lo ha hecho la generalitat catalana que se puede hacer que lo hizo y lo hizo incluso con todo tipo de presos lo conozco de primera mano se puede hacer y eso es lo que nosotras planteamos y ahí es donde discrepo con usted y bueno porque por qué unos van a tener menos derechos y menos oportunidades que otros mire usted ha salido aquí

aquel libro donde venía absolutamente todo usted ha venido otra vez aquí a decirnos que el partido socialista ha hecho de todo sabe de todo y lo tiene todo perfectamente bien hecho pero tienen cuarenta y cinco propuestas

cuarenta y cinco con el partido nacionalista vasco y su consejera ningún modelo ningún papel

pues esto es lo que yo he visto de las cosas que hemos hablando aquí señor zorrilla mire

ha sido muy parecida a otras que he oído más veces ustedes y usted cada vez que hablamos de cosas de transferencias me tiene que dar a mí de que lo hago bien o lo hago mal y que bueno ya era hora de que hayan ustedes venido porque ustedes antes porque es hombre

ya está bien estamos en el año dos mil diecinueve y mire

con la propuesta de euskal herria bildu tan vehemente y traiga propuestas claro el problema es que trae las cuarenta y cinco que tienen ahí y tienen un problema que no tienen otras y parece que no tienen ninguna cosa mejor

pidiendo las transferencias pues o no han sido muy rápidos

en este país que es abreviado pero dura a veces diecisiete años han hecho ustedes un trabajo bastante complicado de explicar han tardado ustedes mucho no les interesaba o no querían yo aquí lo que veo es que el problema es que faltaba el interés y

esto y una última mención a la cuestión de la autocrítica mire autocrítica nosotros hemos hecho hace muy pocos días incluso

ya me gustaría que todo el mundo haga la misma y cuando hablamos de los derechos de los presos cuando hablamos de los principios inspiradores

informe y hablamos de presos en primer lugar porque es que la política penitenciaria la gestión y el tratamiento se dirige a las personas en situación de prisión

y hacemos la división y no engañamos a nadie no tenemos porqué engañar tenemos muy claro lo que queremos porqué lo queremos y porqué lo pedimos

para debatirlo con todo el mundo eskerrik asko goirizelaia

gracias de nuevo señora presidenta y buenos días de nuevo también a todos yo estoy de acuerdo con usted señora goirizelaia entre el original y la copia la sociedad siempre se queda con el original

muchas veces pero usted a mí me parece absolutamente lícito que ustedes propongan este pleno monográfico

cuál es el centro de sus preocupaciones luego le diré de todas maneras también porqué ha elegido o sea ustedes no quieren hablar de política penitenciaria porque existen

quieren utilizar este parlamento como altavoz porque estamos en campaña electoral y evidentemente

lo ha envuelto de embalaje como si ustedes solamente estuvieran hablando de política penitenciaria o como si fueran los únicos y luego me referiré también al señor zorrilla

y les vuelvo a decir lo que les he dicho antes vean la película por qué le llaman amor cuando quieren decir sexo ustedes estoy convencida porque las dos primeras

son las que son son las que son el acercamiento de los presos pero acto seguido los presos de motivación política que le vuelvo a decir

quieren considerarlos como víctimas de la política de estado esas son sus intenciones por qué porque ustedes han utilizado este parlamento hoy como un escenario de una campaña electoral estamos en campaña y usted está en campaña señora goirizelaia

este parlamento el altavoz de este parlamento de este pleno para su campaña electoral y aquí ustedes

las primeras medidas van a ser las que son las de los presos de eta que le repito no son presos de motivación política

por asesinar por extorsionar por secuestrar y ustedes hablan de respeto a los derechos humanos de respeto a las víctimas respetaron los presos de eta los derechos humanos los respetan en este momento cuando siguen guardando silencio impidiendo que más de trescientos atentados se puedan investigar

igual que con los juzgados fenomenal cuando no les da la razón entonces ya ponemos

contrario al artículo tres del convenio europeo de los derechos humanos ustedes que tanto se les llena la boca hablando de los derechos humanos y ustedes

que se denuncien ustedes dicen que a través de directivas de instrucciones se incumple la ley pues se denuncia ese incumplimiento evidentemente existe una jerarquía por eso le decía que ustedes aquí no iban a poder hacer aunque tengamos la competencia no se va a poder hacer

le doy la razón pero no lo podrían hacer aquí porque reglamentos

de si tuviéramos aquí de los datos que hay en las cárceles españolas

vamos porque claro venían aquí venían de invitados nadie le podía nadie le respondía

pintar una situación idílica que fue lo que hicieron cuando ellos también tienen críticas yo se lo dije cuando comparecieron tienen las críticas de abogados catalanes que están diciendo que en las cárceles catalanas no existe trasparencia que se da un trato diferenciado

extranjeros que no pueden comparecer algunos ante el parlamento para poder contar su situación

y once más han muerto por otras causas durante los últimos diez años sesenta y ocho personas se han quitado la vida en algún centro penitenciario catalán dos mil trece ha sido el año más mortal de la última década cuando sesenta y dos personas murieron en prisiones catalanes por varios motivos

en cataluña eso ha impedido las muertes en prisión lo ha impedido con relación

los principios que inspira y también lo ha dicho el partido nacionalista vasco que son la resocialización y la inserción eso qué quiere decir que el sistema penitenciario español no aboga por la reinserción y la resocialización eso lo comparte el partido socialista

durante años de los distintos gobiernos de españa compartidos o alternados por el partido socialista y por el partido popular

de las instituciones penitenciarias el partido socialista no para él la rehabilitación y la resocialización no era el primer objetivo

y con relación yo no sé yo no le he entendido muy bien al partido nacionalista vasco

no sé el interés que yo tenía en este tema que se había demostrado en mi intervención

la he dividido como he considerado pertinente en la primera yo ya le he dicho que he puesto las características del sistema penitenciario español precisamente porque a través del documento de eh bildu lo que se ha intentado poner en solfa todo ese sistema entonces y

las características que tenía que tener el sistema penitenciario ya las tenía en españa nosotros tenemos nuestras propuestas que las vamos a presentar nosotros hemos participado

que es un tema a tratar y usted me hablaba de populismo vomitivo yo me imagino que ese populismo

se refiere es a impulsar la prisión permanente revisable que yo

que estoy absolutamente a favor de la prisión permanente revisable

que la respuesta que tiene que dar el derecho penal tiene que ir acorde con las conductas y a mayor gravedad de la conducta mayor pena y habrá que tener en cuenta

que no están en capacidad de ser durante muchos años

no están resocializadas mire sabe qué me parece a mí vomitivo que el asesino de laura luelmo estuviera

en la calle estuviera en la calle y eso hiciera que la

sí que me lo parece desde luego y considero que la prisión permanente revisable

no es venganza es justicia y ustedes que tanto dicen escuchar a la sociedad parece que y a las víctimas que lo que opinen las víctimas en ese sentido y lo que opinen más de tres millónes de personas

no tiene que ser escuchado pero vamos hablar de competencias señor zorrilla

iba usted a sacar las competencias con la regulación actual ya le he dicho antes gobierno vasco diputaciones y ayuntamientos tienen cuestiones que pueden realizar

y usted fue testigo de dos cuestiones que nos pusieron encima de la mesa dos cuestiones que son responsabilidad de competencias que en este momento se están ejerciendo en euskadi una

no puede salir a la calle porque no existe un recurso social residencial al que le pueden llevar dos un enfermo de cáncer tres cuartos de lo mismo y en los dos casos depende de instituciones que están gobernadas por el partido nacionalista vasco y sobre los que puedan ejercer la competencia se lo he dicho tener la competencia no siempre

mucho tiempo ustedes no reclamaron la competencia no les interesaba no les interesaba les interesaba un comino la competencia de prisiones lo que pasa es que ahora les viene bien a este pleno les viene bien para sumarse al carro

de la bronca con madrid de ese victimismo que ustedes quieren hacer de reclamación continua de las competencias de aquí lo hacemos mejor

de la lectura que el nacionalismo hace de cómo se tienen que interpretar y aquí tuvimos un debate sobre la seguridad social la semana pasada lo dejó bien claro eso sí claro ustedes ante la moción que usted ha citado del senado tienen que rasgarse la vestiduras decir

lo que les endemonia le llevan los demonios es la presencia del estado

aniquilar total y absolutamente el estado porque ustedes van un paso más allá reclaman la competencia

ustedes lo que quieren es la independencia lo que pasa que claro ya les he dicho original y copia el original pide la independencia siempre y en todo momento y ocasión la copia la pide depende de dónde estamos y en qué momento estemos

ya no es tan claro esa petición de independencia yo

lo que nosotros proponemos que consideramos que es un debate importante y que probablemente es un debate que se pudiera haber llevado de manera mucho más sosegada y mucho más útil comisión porque creo que todos tenemos que aportar todos hemos estado presentes en las comisiones y hemos oído a los comparecientes todos hemos visto sus aportaciones y todos hemos escuchado también las aportaciones

del gobierno vasco al respecto y todos vamos a presentar propuestas de resolución

el tratamiento porque desde luego el grupo popular tiene muy claro no solamente porque es un principio constitucional como he dicho recogido en el artículo veinticinco

deben estar dirigidas a la resocialización y a la reinserción

que han tenido penas justas por la comisión de delitos en personas que renuncien
a esa comisión de delitos que se arrepientan de esa comisión de los delitos amaitu mesedez y que se encuentren

no tengan que volver a delinquir y puedan vivir en sociedad libremente nada más muchas gracias eskerrik asko llanos andrea euskal sozialistak castelo andrea zurea da

que le ha molestado que los socialistas sepamos de esto y no solamente usted en esta cámara hombre

y porque yo creo que tiene un interés sincero en esta materia pero no es la única no es la única entonces

o que el grupo socialista cuando interviene coincida con usted en objetivos principios y derechos y entonces lo nuestro no es nada

lo nuestro procede de una reflexión profunda como sobreentiendo procederá la suya ahora eso sí que es cierto

de comentarlas no van al peso son cuarenta y cuatro creo que sí cuarenta y cuatro las suyas cuántas ciento y pico

daña mucho daña mucho y han corrido mucho porque se les había olvidado una cosa básica y era que en su documento no habían puesto ni los principios

a lo que era el meollo de la cuestión suya porque sus primeras medidas muy allá de que nos preocupamos

no nos entiendo en muchas cuestiones esta es otra de ellas yo lo que he dicho es que no hay que engañar y que hay que centrar el debate aunque después cambie con alguna intervención que me ha hecho el señor uria pues no sé yo si hemos centrado mucho el debate porque con esta transferencia no

de cambiar la política penitenciaria que se realiza en el estado español tenemos la capacidad de gestionar

las instituciones penitenciarias con respecto al cumplimiento de la función de resocialización y es conveniente así como ese periodista le costaba entender

quién hace las leyes quién las interpreta y quién las ejecuta también es conveniente que los parlamentarios hagamos un esfuerzo de claridad y no mezclemos las cosas porque eso y equivoca y yo lo que he dicho es que la transferencia lo que nos va a permitir es trabajar con la población reclusa en euskadi que actualmente está en euskadi y las que lleguen posteriormente a euskadi y yo le he dicho también que manifestamos nuestro posicionamiento favorable al arraigo allá donde hay vinculación eso ya se lo he dicho lo que le digo es que usted no engañe porque lo que no vamos a tener porque tengamos la transferencia es un traslado masivo de esos presos que a ustedes les preocupan y les ocupan fíjese si les preocupan y las es ocupan

que tan siquiera tenemos ningún centro penitenciario para primer grado

tenemos no tenemos no tenemos pero como no importa lo que tengamos o no porque usted piensa en lo que está pensando

la propuesta está tan verde pues no sé si está verde o no está verde pero desde luego reflexionada como la suya compartida como la suya aunque le duela si usted cree que son generalidades los principios los objetivos los derechos y los ejes estratégicos

serio y la verdad cuando alguien le dice que el informe está en fase de contraste y que en este momento está en fase de aportaciones también del propio

departamento como mínimo debía de escucharla

y como lo mínimo debería de pedir reflexión y serenidad para cerrar un buen modelo la verdad es que a mí no me preocupa mucho a quién copia y qué usted ha copiado

en sus propuesta los demás hemos copiado claro de quién

día a día y nos han trasladado cuáles son los problemas a los que se enfrentan que por cierto

hablen en euskera o trabajen en euskera me han hablado de la enfermedad mental de una forma muy intensa me han hablado de la situación de las mujeres de una forma muy intensa me han hablado de los problemas de adicción y del tráfico de drogas legal e ilegal

podríamos poner en marcha y también nos han dicho qué limitaciones tenemos por el procedimiento garantista que existe en este momento en el modelo penitenciario español eso lo ha escuchado usted igual que yo cuando hemos ido a un centro penitenciario y ahí no le he oído a usted contrastarle ni tan siquiera echarle por tierra

todo todo digo yo que no está mal en el sistema penitenciario actual porque usted en sus propuestas las que nos va a defender luego

me habla de mantener unidades terapéuticas del sistema penitenciario actual módulos de respeto centros productivos de trabajo para la mejora de la empleabilidad

en el modelo por eso cuando usted dice que quiere transformar de raíz yo no le acompaño en ese planteamiento yo no quiero transformar de raíz yo quiero transformar cambiar innovar modificar y mejorar haciendo tabla rasa de todo lo que viene porque ni lo demonizo ni lo ensalzo simplemente quiero aprovecharlo y creemos como cree la sociedad que se podría gestionar mejor desde los principios que nos inspiran a los socialistas y que seguramente compartimos

una mejor gestión de la política penitenciaria en el país vasco en las instituciones penitenciarias y compartimos que el medio cerrado tiene que ser el último recurso y que queremos el medio abierto pero no hay mejor modelo penitenciario señora goirizelaia que aquel en el que

hay personas que hayan cometido delitos y ustedes durante muchos años pudieron hacer mucho para que no entraran todos esos reclusos pero no quisieron fíjese si no quieren todavía reconocer lo que tienen que reconocer que le siguen llamando presos de motivación política

son asesinos extorsionadores secuestradores eso es lo que son nos son presos de motivación política y no nos lo puede decir ni a los del partido popular

pues no los hemos tenido nosotros no teníamos garantizado nuestro derecho a la vida no íbamos solos por la calle

cuestan y estamos haciendo esfuerzos importantes para ser capaces también de meternos en una burbuja lo suficientemente pura y sincera para avanzar hacia aquellas cuestiones que creemos que tiene que avanzar la convivencia también en euskadi por tanto flaco favor le hace usted con estos discursos encendidos yo sí que creo y lo voy a compartir porque usted decía que las cosas han cambiado

hay un calendario finales dos mil veinte aún a pesar de eso a usted le daba igual quería el pleno monográfico y lo quería en pleno y no lo quería en comisión porque no le interesa lo que vayamos a pactar después

y yo llevo hablando desde hace ya dos días con el resto de grupos parlamentarios ni un solo esfuerzo para que intentáramos saber cuál era la posición de ambas formaciones

de que habíamos tenido todos una muy buena intención para empezar el trabajo la semana pasada bueno la empezamos esta ni una

no les interesaba esto les interesa la propaganda y que ustedes sean los defensores de ese colectivo que es suyo solo suyo que suyo pues hombre nosotros aquí la verdad como no venimos a engañar veníamos con un debate de sinceridad y de utilidad seguiremos trabajando con aquellos grupos que quieran trabajar

de trabajo y justicia aquellos principios aquellas orientaciones que creemos que el modelo penitenciario tiene que tener para ser desarrollado

pues quédense al margen que no les necesitamos eskerrik asko castelo anderea elkarrekin podemos uria jauna zurea da hitza

compañeros y compañeras parlamentarias bueno bueno bueno no hace falta

hemos leído todas las propuestas de resolución de todos los grupos y el nivel de consenso es muy alto a mí no es que me guste

no es necesario exagerar la nota bienvenidas sean las propuestas de la consejera queremos nada más un documento

gracias hay más grado de consenso entre todos los grupos políticos inclusive el pp si leéis las veinte propuestas de resolución que han presentado

todo el mundo está planteando que la seguridad es uno de los problemas estamos hablando de cómo se gestiona la seguridad más policía

más presos y presas por encima de los promedios de los delitos y de su gravedad tenemos dieciséis mil policías cinco mil ciento setenta y uno del estado fuerzas de cuerpos de seguridad del estado ocho mil ertzainas tres mil municipales

solo nos gana montenegro ucrania y polonia un vistacito que he echado código penal más punitivo todavía más prisiones permanentes más presos

compañera llanos todas las personas tienen

permanente no entiendo bien esto de las cadenas perpetuas no entiendo bien esto de los marcos jurídicos que intentan amortiguar las capacidades de gestión autónoma que podemos tener

si no tenemos claro entre todas y entre todos que todas

a organizar sus derechos de otra manera no sé de qué estamos hablando yo creo que

organizativo para que este debate llegue relativamente maduro al pleno y también han hecho lean las proposiciones que han hecho han hecho un esfuerzo en la organización de sus ideas

como el psoe el pnv y el mismo pp si se lee son parte de las propuestas del pp

de justicia y trabajo es rigurosamente cierto entonces qué pasa bien y acabo ya es que tenemos un problema con los problemas de seguridad con la gestión de la seguridad con los problemas de la tipificación de delitos

con un código penal que hay que reformar sin ningún tipo de dudas y sabemos perfectamente alexia compañera alexia sabemos qué es la ley general penitenciaria y qué es la ley penal y que es el código penal

pero no hace falta recordarlo porque ni siquiera tenemos la transferencia no nos recuerdes continuamente los topes que tenemos los vascos y las vascas de organizar nuestra propia convivencia

los responsables políticos de cataluña a nuestra comisión y empezaron a explicar medidas que habían hecho no solamente en gestión sino en infraestructuras en la organización de grados yo les pregunte dice grados grados de los reclusos y

hay margen de maniobra hay voluntad política y solo nos falta un grado de consenso político suficiente insisto conocemos los marcos más o menos constitucionales marcos constitucionales que no van a ser siempre igual

me ha entendido mal y varias cosas además no sé si me he expresado yo mal o la que esta espesa es usted en primer lugar le decía en relación con el interés sobre el tema

planteamiento de su intervención cada parlamentario tiene lógicamente cómo plantear su intervención le hacía una crítica en cuanto al interés del partido popular del tema en dos aspectos en primer lugar porque criticaba al proponente en este caso de eh bildu que este no era un tema de interés para la sociedad según lo que usted interpreta ese era el para usted hay otros temas más prioritarios

y también le decía por el interés que tenían durante su intervención

del grupo creo no voy a hacer un chiste fácil en segundo lugar dice que no les ha interesado al pnv

a propuestas a iniciativas revise el acuerdo de gobierno yo lo tenemos claro cuál ha sido el posicionamiento del pp el del pnv

en mil novecientos noventa y cinco aquí en esta misma cámara votaron a favor de las prioridades del cumplimiento del estatuto y una de ellas era la transferencia de prisiones y ahora

parece que se está volviendo a la posición de alianza popular y unión nacional

que decían que entendían que la autonomía de los pueblos era una amenaza para la unidad de españa quizás

cuál es nuestro posicionamiento y cuál ha sido siempre en tercer lugar hablaba de populismo vomitivo

punitivo que en algunos casos puede ser vomitivo pero es populismo punitivo al que me refería

puede negar pero es evidente que las sucesivas reformas penales que se han acometido con los gobiernos del partido popular han sido regresivas y han llevado a un endurecimiento de las penas y

al entender que la prisión es una sanción penal que hay que utilizar de manera

residual entonces ustedes lo que hacen es la sanción penal darle prioridad marginando las medidas alternativas

la prisión permanente revisable pues yo creo que supone la traición más dura de los principios de reinserción y de dignidad humana decía usted que no es venganza es justicia hombre también la ley del talión podía considerarse como justicia

para los americanos es justicia pero es justa esa justicia dice que hay que escuchar lo que opina la sociedad para tenerlo en cuenta por supuesto por supuesto que hay que escuchar a la sociedad es muy distinto a legislar en caliente o solo escucharla cuando nos interesa y en base a eso de obtener intereses electorales y réditos electorales por otro lado respecto a euskal herria bildu decía la señora goirizelaia que el señor erkoreka no le ha puesto la última en el dos mil veinte

yo creo que el señor erkoreka no le ha puesto la última porque

y una de las dos prioridades es la transferencia de los servicios penitenciarios

que el texto de eh bildu ha sido el elemento central del debate lógicamente los proponentes han sido ustedes entonces han publicado un documento al que le han dado incluso

pero eso no quiere decir que ustedes parezcan el gobierno luego veremos a la tarde las propuestas de resolución dice que más de cien propuestas le decía a la señora castelo esto no se trata de número no de cantidad sino de calidad y veremos también si las ciento quince que ha planteado euskal herria bildu son más coherentes más apoyables que las cuarenta y cuatro que han presentado grupos nacionalista y socialistas vascos

en esta vida todo está inventado y lo bueno se copia pero es malo copiar sobre todo cuando se hace mal

del despropósito yo tenía un compañero en la universidad que fotocopiaba los libros en tamaño reducido y luego suspendía

suspendía dice

la consejera es falta de concreción no sé si lo que ustedes han planteado y luego veremos

ejercer de gobierno una facultad que la sociedad vasca de momento no le ha atribuido y esperemos que no le atribuyan entonces

que en este caso es instar a que se tomen en consideración unas directrices pero están planteando medidas concretísimas como luego veremos

decía que mi intervención pues que ha sido la he defraudado que ha sido parecida a otras uno tiene coherencia y no va a cambiar de opinión ni en el setenta y nueve ni en el dos mil diecinueve ni si tiene coherencia mantiene lo que cree que está bien y sí que está claro lo que quieren yo

ustedes pueden vestirlo como quieran y están en su legítimo derecho pero hay un documento como hemos dicho con unas prioridades claras el primer punto acercamiento de presos segundo bloque medidas para evitar la excepcionalidad con presos de motivación política como decía antes de la situación de las mujeres de las medidas

eso está claro las declaraciones son evidentes tiene aquí una suya bildu

esas declaraciones de bildu en la ponencia de memoria ustedes querían centrar el debate los presos su objetivo eran los presos y el programa electoral que ha mencionado también

legislatura y el punto cinco dice asunción de competencias penitenciarias con lo cual

pero dice a continuación dice la estancia de los presos vascos en prisiones vascas

una nueva política penitenciaria alternativa en ejecución de la competencia de prisiones no no la transferencia tiene que venir a euskadi y se gestionará para aplicar a todas las personas privadas de libertad que están en las cárceles vascas y también como decía antes para los presos y presas de eta finalmente decía que

los ongi etorris las bienvenidas a lo que hemos venido diciendo otros grupos

decía que estábamos que llevamos cuarenta años pidiendo las transferencias pues sí por coherencia llevamos cuarenta años

entonces si ustedes hubieran apoyado nuestra petición de transferencias probablemente hubiéramos avanzado más y si no hubiera estado el fenómeno del terrorismo probablemente aún más

escrita del consejero de gobernanza a pregunta suya que le explica tanto jurisprudencialmente como el mecanismo de convocar la comisión mixta y no depende de nosotros depende del gobierno español por lo tanto lo sabe claramente cuál es el procedimiento en cuanto a la autocrítica bueno pues se ha salido un poco por dice que etxerat ya ha hecho

yo no sé etxerat no está aquí no es grupo parlamentario de momento bienvenida la

a euskal herria bildu y más concretamente más concretamente porque dentro de euskal herria bildu hay grupos que sí lo han hecho

es un representante evidente por lo tanto decía que estamos que nos olvidemos

y no nos olvidamos de lo pasado porque izan zirelako gara eta garelako izango dira y para finalizar respecto a la exposición de la señora consejera pues bueno valorar el trabajo

la disposición y el apoyo de nuestro grupo parlamentario para llevarlo adelante porque creemos que es un trabajo bien orientado